zerbitzuek ematen dizkigute ahalmenak aprobetxatzeko es por eso que de las doce líneas de actuación de las cincuenta y dos iniciativas

acciones concretas que contempla el plan del que se nos ha dado cuenta nosotros querríamos centrarnos para conocerla con mayor detalle en una de las acciones que consiste en dotar a los y las agentes de cámaras de seguridad para poder así grabar sus actuaciones profundizando en la transparencia y garantizando y preservando así el buen nombre

es la siguiente cuál es la previsión del departamento de cara a la efectiva implementación de esta medida eskerrik asko eskerrik asko

sartzearen inkorporatzearen inguruko proiektuari un proyecto que cuyo sentido

transparencia y garantía o si prefieren más transparencia y más garantía porque el proyecto lo que persigue es mejorar la transparencia de todas y cada una de las actuaciones de la ertzaintza aportando garantía garantía en primer lugar a la ciudadanía a las personas que van a ser objeto destinatarias de esas grabaciones

infundadas falsas o que no se corresponden con lo que esas personas han dicho o he hecho realmente garantía en segundo lugar para

claramente qué es lo que dijeron y lo que hicieron y qué es aunque les atribuyan lo que

en tercer lugar garantía para el propio sistema para el sistema de seguridad por supuesto pero sobre todo para el sistema judicial porque de esta manera se harán aportaciones

a efectos probatorios de cara a determinar a esclarecer los hechos y de cara también a poder identificar a las personas que intervinieron en una determinada acción todo ello

respeto a las normas que regulan la protección de datos de carácter personal y por supuesto siempre avisando con carácter previo la puesta en marcha de los mecanismos de grabación

ilimitadas indiscriminadas y sistemáticas sino de grabaciones que tendrán lugar en situaciones concretas cuando se produzcan y se puedan constatar riesgos y peligros concretos

que nos permitirá habilitar un plan piloto que funcionará en el último trimestre de este año a tal efecto se destinarán treinta cámaras con baterías de doce horas de duración cada una a agentes que se situarán

concretamente serán dos cámaras por cada uno de los tres turnos de patrulla mañana tarde y noche en bilbao vitoria gasteiz e irún que son los lugares en los que se plasmará el plan piloto aunque en el caso de bilbao habrá un dispositivo reforzado para atender específicamente la zona de san francisco

descarga automatizada de las imágenes y sobre todo de posterior gestión de los vídeos

total seguridad y a efectos también de cumplir estrictamente la normativa que establece su destrucción

si el plan piloto tiene éxito esperemos que así sea es objetivo del departamento ir avanzando progresivamente en la implantación de estos dispositivos en el conjunto de las patrullas de la ertzaintza de cara que hacia el final de la legislatura

avanzado que ofrece como antes he dicho sobre todo transparencia y garantía actuaciones

lo está pasando tan mal que no vale racanear con los recursos del gobierno

disponible y esto no hay quien lo entienda y esto se puede solucionar aquí sin mirar a madrid

y esto se ha convertido además en un debate que cambia el foco de lo fundamental que es un virus que está mandando a cientos de personas a los hospitales

erabiltzea utilizar todos los recursos todos los instrumentos políticos y jurídicos disponibles con la mayor eficacia creemos que contamos con algunos de ellos

yo me siento orgulloso del sistema vasco de salud la tasa de incidencia es alta sí porque en euskadi es donde más test realizamos

menos personas que la media del estado después de casi catorce meses esto es lo importante más test más rastreo

más atención primaria para seguir reduciendo las personas enfermas y fallecidas usted plantea alianzas políticas y hace referencias a los errores

o al marco yo creo que la ciudadanía tiene que saber que además de las decisiones que se adoptan los plenos ordinarios de los jueves aquí que muchas de las decisiones

todos los miércoles hasta la semana pasada ha habido reunión con todos los grupos parlamentarios donde todos los grupos parlamentarios han podido hacer sus aportaciones

rico jauna zurea da hitza gracias señora presidenta señora vicelehendakari

de mayo y por segundo año consecutivo no podemos celebrarlo como a los socialistas nos gustaría como una fiesta que llene las calles de solidaridad obrera

muy especial porque la primera vez que los vascos fuimos llamados a esta cita fue hace ciento treinta y uno años por iniciativa del partido socialista fue hace dos años fue dos años después de que esta fecha se ideara en la segunda internacional cuatro años después de que en

y cuatro años después también de la fundación de la primera agrupación socialista en esta tierra lo que nos han convertido

por eso es tan importante para nosotros el primero de mayo porque fue el primer paso para llevar las cosas de los más vulnerables a las instituciones los socialistas se sumaron a ese evento internacional y la respuesta fue dura pero la consecuencia fue que también se trajo aquí la reducción

pero lo más importante es que los trabajadores vascos tomaron conciencia de su capacidad para cambiar las condiciones en las que vivían y trabajaban

instituciones un año después el primer obrero llegó a esas instituciones

en el ayuntamiento de bilbao pudo ser concejal porque tenía una carbonería y el régimen de la época le consideró propietario hubo tres electos más

hoy los trabajadores y las trabajadoras se enfrentan a nuevos retos en un mundo en constante transformación que la crisis no ha hecho nada más que acelerar

y la necesidad de contar con perfiles profesionales adaptados a los cuidados la automatización acelerada de muchos trabajos la transición energética que obliga a empresas

todo eso estaba en la agenda la pandemia nos ha obligado a establecer prioridades pero sin olvidar los retos del futuro por eso los socialistas nos hemos comprometido a fondo en esta legislatura a atender lo urgente el rescate social y económico de euskadi

lo más importante que es la transformación de ese mundo que nos rodea por eso nos parece especialmente relevante

pero que parte con realismo de la situación que vivimos en la actualidad tendremos ocasión de debatirla en la comisión del parlamento vasco porque la vicelehendakari

que marcará las políticas de empleo de este gobierno y de las dos próximas legislaturas pero nos ha parecido especialmente relevante que en esa estrategia nos sale de un nuevo derecho el de las políticas activas de empleo

y nos parece relevante no solo porque en el pasado hemos sabido construir derechos como el de la salud la educación la rgi o la vivienda en los que siempre hemos tomado parte los socialistas en muchos casos llevando la propia iniciativa

una salida justa a esta crisis se les abre una puerta

por eso le preguntamos a la vicelehendakari cuáles son sus intenciones en relación a este nuevo derecho a la formación y la activación para el empleo eskerrik asko rico jauna

el concepto se aprobó en naciones unidas en el año dos mil quince donde todos los países aprobaron los objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo ocho se refiere precisamente al trabajo decente a las condiciones para acceder a un empleo que se considere de calidad pero el cuatro se refiere también a las competencias profesionales y en el año dos mil diecisiete fue la propia unión europea la que en la cumbre de gotemburgo sintetizó

a las condiciones completas en las que debemos entender el empleo y en su punto cuarto dice toda persona tiene derecho a recibir asistencia personalizada y oportuna a fin de mejorar sus perspectivas de empleo de trabajo autónomo y esto incluye el derecho a recibir

toda persona tiene derecho a la transferencia de la protección social

lo que nosotros hacemos es utilizar las herramientas a nuestro alcance que son las competencias en políticas activas este nuevo derecho pasamos de gestionar competencias a transformarlas en una herramienta exigible por parte de los trabajadores y ese derecho lo va a tener que garantizar lanbide

para que cuando este parlamento apruebe la ley de empleo en la que se definirá ese nuevo derecho esté preparado para hacerlo posible mi departamento es consciente del reto tan solo existe de momento alguna experiencia en europa y ninguna en españa

está acelerando muchos procesos de transformación de nuestro tejido productivo y cuando salgamos porque vamos a salir queremos que sea de una forma justa y sin que nadie se nos quede atrás tampoco ningún trabajador porque no haya tenido la opción o los recursos para acceder a la formación que necesitaba tenemos la convicción de que en el futuro esta va a ser una clave esencial para mitigar la desigualdad

sino para todas las personas el acceso a la formación y a las oportunidades de empleo también tienen que tener la misma consideración porque un empleo de calidad es la llave que debe abrir la puerta a la inclusión social de cada persona es por tanto la llave de cohesión de una sociedad y la cohesión debe ser una causa justa es un factor de competitividad y de progreso vamos a tener tiempo de contrastarlo como muy bien señalaba en este parlamento invitar a todos los grupos a que se sumen a esta oportunidad de sumarse a esta estrategia con sus propuestas con un debate enriquecedor y positivo y levantar juntos la mirada hacia el futuro

todo el mundo vivía confinado entre las cuatro paredes de su casa con el miedo y la incertidumbre

solo salíamos para hacer las compras necesarias para ir a la farmacia

quien pudiera para aplaudir al personal sanitario por el esfuerzo titánico para agradecer el esfuerzo titánico que estaban realizando en los hospitales

desconocido y un año después estamos en las mismas cifras un año después volvemos a tener un sistema sanitario que está al borde del colapso

no nos cansamos de decir que necesitamos y pedimos al gobierno

atajar las desorbitadas tasas de temporalidad y también reforzar los recursos de la sanidad pública cuando comenzó la pandemia nos encontró en una situación estructural con una plantilla

que seguimos con el mismo problema estructural horregatik esaten dizut ardura

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora gorrotxategi yo le pediría que cuando haga referencia a

y en lo que afecta a lo que es la presión asistencial sanitaria en los hospitales también

completa con respecto a lo que fue el ejemplo de gestión y está siendo el ejemplo de gestión en los hospitales vascos en comparación con los hospitales de otras comunidades autónomas

edo indiakoa y sin embargo yo creo que tenemos razones para una mirada positiva señora

la tendencia ascendente de las últimas semanas se ha detenido las autoridades científicosanitarias de la comisión técnica han expresado en su dictamen la convicción de que esta estabilización precede a una fase descendente hemos avanzado en la vacunación y las próximas semanas lo haremos mucho más

avanzamos a buen ritmo con las personas entre sesenta y ochenta años la situación sanitaria efectivamente sigue siendo grave y preocupante pero estamos preparados estamos preparados y tenemos recursos para afrontar con buenos resultados el último tramo de esta maratón como lo hicimos el año pasado creo que hace falta mucha humildad para enfrentar con rigor esta pandemia que hay que aprender

lo que no se sabe que hay que aplicar un modo honesto de ensayo error que hay que atender las recomendaciones sanitarias expertas y buscar la colaboración supongo que esto es aplicable en todo el mundo no hay más que analizar la gestión de los gobiernos de esta pandemia en cualquier punto del planeta señora gorrotxategi yo en esa valoración global

también requiere una mirada global no es buen criterio extraer conclusiones por ejemplo como se hace comparando los datos de un día o de una semana entre comunidades por ejemplo se pone de referencia estos días valencia que tiene buenos datos pero en febrero su tasa por ejemplo

casi el triple de lo que hoy tiene euskadi también se pone ahí como ejemplo navarra ahora

desde el inicio de la segunda ola todas las comunidades han alcanzado en algún momento todas tasas de incidencia superiores a las registradas en euskadi

a la estigmatización que se pretende de euskadi habría que añadir aragón cantabria madrid melilla navarra la rioja o cataluña he querido compartir con usted

agradezco siempre sus palabras de disposición a la colaboración y espero que en ellas podamos profundizar eskerrik asko

de alarma a la carta que proponía la señora mendia pero los vascos ya conocemos su menú un menú desgraciadamente que incluye hoy hoy la peor situación de españa y la peor de europa en contagios las mayores restricciones en la economía y el empleo con los peores resultados frente a la pandemia cartas sin respuesta de su socio el señor sánchez y todas las divisiones y contradicciones posibles en su gobierno sobre cómo afrontar el futuro casi cada veinticuatro horas

de la situación ante el inminente fin del estado de alarma lehendakari jauna eskerrik asko iturgaiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz si quiere y si necesita le repito los datos que antes he ofrecido en la pregunta respuesta anterior

a mí sí me gustaría recordarle mire el señor sánchez su socio ha perdido un año sin ponerse

para hacer frente a esta pandemia todos lo sabemos sánchez

o lo que se suele decir en román paladino sánchez como el perro del hortelano ni come ni deja comer en su gobierno señor urkullu como le he dicho anteriormente usted pidiendo prorroga del estado alarma y la señora mendia estado de alarma a la carta quizá por eso su socio

es por lo que dicen que usted se cartea con el señor sánchez como lehendakari como lehendakari

naturalmente el señor sánchez ha dado la callada por respuesta a su carta

puro ninguneo como de costumbre y hoy yo en cambio quiero hacerle a usted una propuesta lehendakari una propuesta que espero que mi propuesta no le parezca esa sarta de barbaridades que siempre nos dice a mi coalición cuando estamos en esta

en esta tribuna porque de verdad que el atolladero de sánchez tiene remedio

que presentó el partido popular un plan para afrontar reformas rápidas de leyes y asistentes para habilitar

un plan bien visto por cierto por portavoces también de su partido y que permitiría resolver las dos cuestiones fundamentales y esenciales que ustedes las conocen las restricciones a la movilidad

es mucho más urgente que usted respalde ese plan b por la cuestión de tiempo que la aprobación de su ley antipandemia y probablemente probablemente más eficaz por supuesto más responsable y solidario desde mi punto de vista ante la sociedad vasca y el conjunto de los españoles

a que aproveche la tribuna y asuma ese compromiso

porque visto lo visto el presidente del gobierno no puede ningunearle a usted más así que

el interés de los vascos no es vivir permanentemente la excepcionalidad constitucional aunque a usted le parezca más sencillo el interés de los vascos es contar con un plan b el día nueve aunque eso requiera hablar con nuestro grupo aquí o en madrid horregatik

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz usted habla de diferencias en un gobierno de coalición bueno yo le voy a pedir que primero empiece por su propia casa de acuerdo ustedes dentro de su propia casa porque ayer mismo la junta de castilla león presidida por el partido popular solicitaba la prórroga del estado de alarma

plantea en el congreso de los diputados tendrá un tiempo de tramitación y que no llegará en ningún caso antes del nueve de mayo y además el planteamiento de prórroga del estado de alarma avalado también por el presidente de la xunta de galicia habla usted de diferencias en el seno de la coalición de gobierno mire señor iturgaiz pues curiosamente

en la petición de prórroga del estado de alarma de una manera o de otra manera y yo le voy a leer

es por ello que ante el riesgo de inseguridad demoras en la efectividad y por la inquietud del riesgo de interpretación social de posibilidad de vida sin restricciones en un tiempo en el que persiste la incidencia grave de la pandemia solicito la prórroga del estado de alarma hoy vigente mostrando mi voluntad de acordar

en virtud de su aplicación por medio del mando y gestión de las correspondientes presidencias de cada comunidad autónoma de forma coordinada en el conjunto del estado

y del empleo en el plan bizi berri para la respuesta comunitaria estamos de acuerdo en ampliar los acuerdos para la ley vasca de medidas

de acuerdo en buscar un contexto de seguridad jurídica para la adopción de medidas preventivas y restrictivas

estamos de acuerdo en seguir colaborando y explorando las vías del diálogo y la colaboración para alcanzar acuerdos útiles del gobierno español el ministerio de sanidad el consejo interterritorial y también con el resto de comunidades autónomas usted habla de contradicciones pero ya adelantaba la semana pasada o hace quince días que va a recurrir la ley vasca al constitucional y a su vez esa vía

le recomiendo que lea la ley de galicia y el dictamen del consejo de estado

esta pandemia pero contribuirá a que nuestras capacidades de actuación se vean dotadas de mayor solvencia y seguridad jurídica

y me gustaría que pudiéramos contar con su colaboración ya que se ha ofrecido me gustaría que pudiéramos contar con su colaboración y no con esa obstrucción permanente hasta la fecha

como autoridad delegada que soy según el decreto del estado de alarma yo vuelvo a solicitar la prórroga del estado de alarma o bien

a las decisiones le recuerdo que tanto ahora como en octubre comunidades gobernadas por su partido han apoyado la solicitud de prórroga del estado de alarma

mire los datos sí los datos indican también según el consejo interterritorial de aragón cantabria cataluña valencia galicia melilla murcia la rioja

al menos el veinticinco por ciento de los presos de la organización terrorista eta cumplen ya condena en cárceles del país vasco y desde que en junio del dos mil dieciocho el señor sánchez llegara a la presidencia del gobierno de españa

los terroristas reclusos que han sido trasladados a cárceles próximas a euskadi y recientemente hemos tenido conocimiento de supuestas irregularidades en algún permiso penitenciario otorgado por la autoridad judicial competente a reclusos de eta lo que nos lleva a preguntarle señor erkoreka si su departamento con la transferencia de prisiones en la mano

en las prisiones vascas le repito que sí porque si no de lo contrario estaríamos cometiendo un delito de prevaricación y vamos a cumplir estrictamente la ley eskerrik asko

aitor aguirrebarrena fue miembro del comando toto de eta además muy activo durante los primeros años de este siglo se le considera responsable al menos de tres asesinatos los del periodista lópez de la calle y los de dos guardias civiles

además de haber participado en numerosos atentados con explosivos dentro y fuera del país vasco huido a francia hasta su detención cumple hoy condena en una prisión

es uno de esos presos que han firmado un documento tipo en el que dicen reconocer el daño causado y en el que aseguran renunciar a la violencia y estar dispuestos a resarcir a las víctimas

nos han informado de que este recluso disfrutó de un permiso penitenciario el pasado diecinueve de marzo para reunirse en lizarza con sus familiares según la información de la que disponemos

se prolongó algunas más no menos de tres con el visto bueno del responsable del operativo policial que le acompañaba

si también lo es cuando los destinatarios son presos que no son de eta confío en que ustedes puedan desvelarnos si es una extensión normal del permiso concedido

imprudente de los agentes que tenían que velar por lo dispuesto por el juez en vox defendemos que hay que ser especialmente rigurosos en el cumplimiento de las penas impuestas a los presos de eta más si cabe en el caso de quienes han cometido crímenes de la gravedad de los que ha cometido el señor aguirrebarrena y somos especialmente intransigentes porque aún hay trescientos setenta y nueve crímenes de la banda terrorista sin resolver

además de una decena de desapariciones en manos de presos como este señor está la resolución definitiva de muchos de esos casos colaborando con la justicia demostrando que de verdad hacer una reflexión crítica de su pasado violento

que ese documento al que me he referido no les compromete absolutamente a nada que solo es una puerta que han de cruzar para gozar de permisos como el que hoy debatimos en esta cámara

relacionado con la actual crisis sanitaria al parecer en el encuentro que aquí relato participaron no menos de catorce personas superando en casi cuatro veces el máximo impuesto por ustedes mismos para las reuniones en el país vasco tiene algo que decir al respecto de esta cuestión ha ordenado usted la apertura de una investigación interna para saber qué ha sucedido

para que sean instancias judiciales las que decidan qué se ha de hacer para que dirijan la correspondiente investigación

y se determinen las responsabilidades en las que se puede haber incurrido venimos advirtiendo desde hace semanas del riesgo de una gestión de las prisiones vascas en manos del gabinete urkullu del peligro real de que la dirección

con respecto al resto de la población en euskadi hoy traemos a esta cámara una muestra
de lo que en el futuro próximo puede ser habitual eskerrik asko martínez andrea

mahaiburu andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on señora martínez igualdad justicia y políticas sociales será el departamento

en materia de instituciones penitenciarias y no voy a entrar a su juego ni al trapo señora martínez yo no soy tan ingenua como para pensar que la fórmula y la pregunta que nos ha formulado

cuestiones técnicas sabemos que vox solo quiere confundir tergiversar la realidad y retorcerla

somos conscientes de que las declaraciones de vox sobre esta transferencia van a ser siempre irresponsables graves y desmedidas y no voy a perder el tiempo

también seremos responsables de la ejecución de la legislación penitenciaria

la ley orgánica general penitenciaria y la ley orgánica del poder judicial y esta legislación es de aplicación

el código penal dice que no se puede ejecutar una pena o una medida de seguridad en otra forma que la prescrita en la ley

se ha de realizar bajo el control de los jueces y tribunales competentes esto es el juzgado central de vigilancia penitenciaria y las diferentes salas penales de la audiencia nacional la ley orgánica general penitenciaria señala que la actuación

se debe desarrollar con las garantías y dentro de los límites fijados por la ley los reglamentos y las sentencias judiciales y esta ley orgánica añade que esta actuación deberá ejercerse sin establecerse ninguna diferencia y toda esta actuación también cuando sea asumida por el gobierno vasco estará y está sometida al control de los juzgados y de los tribunales y conviene recordar que el reglamento penitenciario

y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas

barneratuta dauden beste pertsona batzuekin egiten denaren berdina izan behar du y por tanto como le decía y en cumplimiento estricto de

el tratamiento penitenciario de las personas privadas de libertad que han cometido delitos de terrorismo como miembros de eta

que el que se realice con otras personas que estén internadas por otros delitos el gobierno vasco va a ejercer esta competencia en cumplimiento estricto de la ley como no podía ser de otra forma y dicho esto señora martínez quiero dejar constancia de que todas las personas presas tienen derechos derechos que están reconocidos en la constitución española

no puede entenderse como un agravio a las víctimas tanto yo como este gobierno hemos demostrado y seguimos trabajando

de acompañar a las víctimas y de promover su reconocimiento legal institucional y social y seguiremos y seguimos luchando y somos firmes defensores

defendemos la promoción de los derechos humanos en la denuncia de sus conculcaciones y vulneraciones
y en la defensa del principio de todos los derechos para todas las personas eskerrik asko artolazabal andrea

lantzen ari garena dos ha sido necesario un nuevo modelo de gobernanza ante la crisis

así se han establecido nuevos marcos de comunicación colaboración y gobernanza multinivel

un modelo de cogobernanza efectiva la información a esta cámara ha sido y es permanente y lo seguirá siendo mientras dure la crisis desgraciadamente este nuevo marco no ha evitado una sobreexcitación de la crítica política en lo que sin duda se puede calificar como utilización partidaria de la pandemia tres la prioridad de la gestión sanitaria desde el primer día fue necesario hacer frente a graves problemas en el ámbito de la atención sanitaria en los primeros meses sufrimos escasez de epi mascarillas respiradores o material sanitario

comprobamos también la necesidad de incrementar la capacidad de realización de test cribados y rastreos así como la reorganización hospitalaria para responder a la presión asistencial de camas y plazas uci los problemas han existido pero cada uno de estos problemas ha encontrado una solución efectiva en un tiempo razonable

evitando cualquier situación de colapso ha actuado siempre con recursos propios y además euskadi ha sido solidaria

en esta misma situación estamos también ahora con un sistema de salud tensionado al máximo pero que resiste gracias a su fortaleza fruto de años de consolidación y al esfuerzo

plan bizi berri y nueva cultura para la vida en comunidad lo desconocido e imprevisible de esta pandemia hace muy difícil trabajar con una previsión de evolución clara superior a las dos semanas

actualizado por la comisión técnica del labi bizi berri nos ofrece una base para orientar la nueva cultura de la convivencia y la vida social en el escenario post covid

nueve rigor y corresponsabilidad social sobre la base de bizi berri se han publicado órdenes o decretos que han ofrecido a la sociedad

explicación y comunicación a la ciudadanía con campañas específicas de concienciación tenemos que reconocer que a pesar de la innegable fatiga pandémica es encomiable la actitud de rigor y corresponsabilidad que está prevaleciendo en la sociedad vasca diez la respuesta de la vacunación han pasado cuatro meses desde que comenzó la campaña de vacunación un camino complejo

las dudas en el suministro no permiten realizar una planificación con garantías y generan cierta ansiedad comprensible entre la población con todo

hoy osakidetza está administrando todas las vacunas que recibe y esta realidad está suponiendo un gran alivio social

este es en síntesis el recorrido de estos catorce meses de respuesta a una pandemia larga dura y desconocida es comprensible sí el cansancio social pero hay que reconocer el esfuerzo del gobierno en mantener un equilibrio a la hora de decidir las medidas a adoptar en este contexto

el nueve de mayo esta situación puede generar incertidumbre

sin este paraguas las restricciones a la movilidad por ejemplo una de las medidas que han resultado más útiles no podrían aplicarse lehendakari

zuzeneko ondorio positiboak dituztela esan nahi baitu el esfuerzo y el cumplimiento de las medidas por parte de la sociedad

muy especialmente en el objetivo primordial reducir al máximo la incidencia de la enfermedad para preservar lo más preciado que tenemos la vida este es el objetivo común reducir las personas fallecidas a lo largo de esta pandemia

que los anteriores el último proceso de su vida en el que estamos se inició el once de marzo desde entonces el pico de positivos se produjo

la tasa parece haber tocado techo este pasado lunes

se ha comportado de modo diferente a las dos anteriores la inclinación de la curva ha sido menos vertical y el pico más bajo pero su duración ha sido mayor

han podido incidir en este comportamiento diferente junto a ello debe considerarse la influencia de la suplantación prácticamente tota

ahora se añaden la incidencia de la variante sudafricana así como algo la brasileña y la india sin influencia por el momento

dijimos que no se trataba de medidas pensadas para unos días sino proyectadas para ser útiles durante semanas

como la que estamos padeciendo con medidas para localidades con tasa superior a cuatrocientos casos el valor de estas medidas es que no son estáticas el rigor de las mismas se incrementa conforme la situación empeora y se atenúa cuando mejora si la evolución de la pandemia ha sido una pauta similar a la de fases anteriores es previsible que asistamos

es fundamental que esta previsión positiva se pueda promover y confirmar en primer lugar para avanzar todo lo posible en el proceso de vacunación en segundo para que la reducción de la incidencia conduzca la distensión y la presión sobre

llegamos al pico de esta fase con un alto grado de presión en la ocupación hospitalaria y de camas uci estamos en el escenario tres sobre cinco

es previsible que la tasa baje las próximas semanas pero la presión sobre el sistema sanitario se mantendrá durante el mes de mayo estamos preparados

nuestro objetivo prioritario es volver al escenario uno en relación con las uci cuantos menos contagios menos ingresos hospitalarios

mantenemos el objetivo de volver a la situación de doscientos casos por cien mil en el más breve espacio de tiempo para lograr este objetivo

con un marco jurídico claro de actuación que permita seguir aplicando medidas eficaces además hemos vacunado en tres meses a los colectivos prioritarios residencias personal sanitario sociosanitario mayores de ochenta años tenemos la esperanza fundada de que este segundo trimestre la vacunación puede avanzar con menos contratiempos

si se mantiene el suministro podemos conseguir que antes del verano la población mayor de cincuenta años este vacunada y esto podría reducir muy ostensiblemente la ocupación actual

la clave de la esperanza se encuentra en la combinación de estos dos objetivos reducir la incidencia del virus a mínimos y llevar la vacunación a la población a máximos

con un equipo ahora más que nunca todas las personas tenemos que concentrarnos en contribuir al logro de estos dos objetivos debemos cumplir todas las medidas

en este sentido la comisión técnica del consejo asesor del labi subraya una preocupación aunque no de modo mayoritario detecta que en sectores de la sociedad crece una pérdida de respeto por las medidas básicas de autoprotección

relajación imprudente sumamente peligrosa observa a grupos de personas que desdeñan la distancia interpersonal de metro y medio en cualquier ámbito o la restricción de agrupación a un máximo de cuatro en las terrazas es cada vez más habitual el no uso de la mascarilla o su uso inconstante

aprecia la comisión técnica una despreocupación por el hábito de ventilar los espacios interiores

de que son seguros los encuentros entre personas no convivientes en domicilios o espacios privados la recomendación de la comisión técnica es unir fuerzas para reiterar la importancia decisiva de las medidas de prevención

distancia interpersonal de metro y medio siempre y en todo ámbito y lugar

evitar situaciones de relación prolongada con no convivientes y ventilación constante de espacios interiores si cumplimos con rigor y avanzamos en la vacunación aliviaremos el sistema sanitario y recuperaremos una vida con menos restricciones

en todo caso cada día vamos cercando más al virus y mejorando la respuesta aquí y en el resto del mundo ahora bien como sucede con otras infecciones o con otras pandemias tampoco en esta nos escapamos de las

o enfermedades oportunistas al igual que estas hay quien aprovecha oportunamente la situación de bajas defensas o debilitamiento del sistema inmunológico

desgraciadamente estos catorce meses hemos tenido demasiados ejemplos de ataques oportunistas que han creído apreciar que este era el momento oportuno para debilitar y si fuera posible acabar con el gobierno son quienes hasta en los momentos más delicados y difíciles ponen sus propias obsesiones e intereses particulares por encima del interés general

es justo reconocer la perseverancia y el tesón en el trabajo gobernua lanpetuta eta gizarte osoaren osasuna zaintzera bideratuta dugun bitartean

respaldo y colaboración una actitud que reconoce a un gobierno centrado en el objetivo de preservar la salud personal y la salud pública

centrado en sostener con equilibrio nuestra economía y empleo para lograr una más rápida recuperación cuando la enfermedad pase

la sociedad necesita también una visión positiva un mensaje de esperanza

parece que hay también razones para ello lehendakari aunque nunca faltan los agoreros del apocalipsis permanente que no hacen más que destacar lo negativo e incluso

al gobierno le toca seguir trabajando gestionar con rigor

sabe que para ello cuenta con todo el apoyo de este grupo y del pnv en su conjunto la trayectoria demostrada y la situación actual

el primer ejemplo es la capacidad de respuesta del sistema vasco de salud

primero en euskadi se realizan más test esto es prevención

somos la comunidad del estado que más test realiza euskadi solo en la última semana

casi el doble de los mil novecientos de media en el estado hacer más test a tasas de incidencia más elevadas cierto pero lo importante es que permite controlar mejor la transmisión del virus evitar nuevos contagios

e ingresos en uci en último término supone reducir los fallecimientos segundo en euskadi se producen menos contagios

la media en el estado siete por ciento de la población contagiada en euskadi cinco coma nueve por ciento por ejemplo en madrid

menos personas contagiadas y que han padecido la enfermedad tercero en euskadi se ha contenido más el incremento de personas fallecidas todo lo que hacemos está orientado a un fin

datos del ine un veinte coma nueve por ciento de incremento

semanas de pandemia con respecto al periodo anterior en euskadi el incremento es del once coma nueve por ciento casi la mitad

un incremento del cuarenta y uno coma dos por ciento hemos realizado más test y hemos logrado reducir las personas contagiadas y fallecidas por qué porque las medidas adoptadas han sido adecuadas porque la sociedad

erantzunak eskaintzen ari gara eta laguntzen helburua egoera ahulenean daudenei laguntzea da el tercer ejemplo corresponde a la comunidad educativa

alumnas y alumnos familias responsables de los centros han hecho posible mantener la educación presencial este logro se valora en mayor medida cuando escuchamos

como francia o israel han tenido las escuelas o universidades cerradas hasta hace unos días euskadi ha logrado mantener las aulas de las escuelas la formación profesional y las universidades abiertas más del noventa y ocho por ciento de las aulas han permanecido abiertas durante todo este curso este logro

social y laboral ha permitido mantener la conciliación o ha supuesto una aportación para los servicios de comedor o el transporte por ejemplo

mi reconocimiento por lo tanto y agradecimiento a la comunidad educativa por su compromiso

horrelako loturak edo horrelako jarrerak eskuma muturrarekin existitzen ote diren porque estoy realmente preocupado porque escuché al líder de esta asociación de esta empresa mafiosa fascista desokupa diciendo que prepararon aquel operativo junto con la ertzaintza y yo no le quiero creer a este líder

creerle al consejero que me explique concretamente cómo se diseñó aquel operativo en abadiño y no quiero que contemporice

explicación plausible de cómo prepararon este

había alguna forma de colusión con esta empresa o con esta asociación y quiero que me explique y no quiero que contemporice

me responde que es una asociación de policías norteamericanos jubilados pero es que es algo más mucho más señor erkoreka porque es una asociación es un grupo supremacista racista que además busca la impunidad de policías estadounidenses que han cometido gravísimas vulneraciones de derechos humanos y ustedes en cierta manera justifican el que este

lo justifican y a mí me da la impresión de que por esa pendiente resbaladiza se conduce al precipicio

y están infiltrando policías otras policías y lo que quiero saber es también si están presentes si se están infiltrando en la ertzaintza porque me preocupa muchísimo

el de corea del norte yo jamás le diría a usted que su modelo policial

pero sí que vemos que hay algunas actitudes que nos preocupan mucho y la ertzaintza no está libre de verse parasitada por estos sectores ultraderechistas

con componente racista y vemos que en algunas ocasiones exhiben símbolos fascistas y en algunos casos reciben instrucción también por oscuros organismos como el batallón de operaciones policiales especiales de brasil y no se puede ser neutral señor erkoreka ante estos
hechos entre el fascismo y el antifascismo eskerrik asko no hay punto de intermedio eskerrik asko eskerrik

y en los términos en los que usted la ha hecho usted ha citado dos casos

usted me ha hablado del caso desokupa le voy a dar le voy a hacer una afirmación rotunda

con la empresa desokupa no tuvo ninguna relación ni antes ni durante ni después de los acontecimientos de abadiño ni antes ni durante ni después es cierto que la ertzaintza estuvo presente allá cuando a instancias del propietario del local

diciendo que había un grupo de personas que estaban haciendo insultos y amenazas por ese motivo se presentó una patrulla e identificó a los concurrentes pero con la persona con la empresa con esa empresa que la ertzaintza ni conocía

no tuvo ni al principio ni durante ni después absolutamente ningún contacto por tanto

que han podido pero es una patraña que no tiene ningún fundamento por lo que se refiere a la

independientemente de lo que digan sobre lo que es esa entidad esa asociación americana yo he ido donde hay que ir cuando se tiene que operar con rigor y con seriedad a la página web oficial

dice que se trata de una asociación de policías y expolicías americanos

reivindicar su buen nombre y solicitar a los poderes públicos que los ataques contra las policías americanas

es un planteamiento que se puede compartir o no es un grupo un colectivo

cada uno verá exactamente si las personas que forman parte de esa organización y el modo en el que se conducen es atractivo o no lo que no tiene ninguna duda es que se trata de una asociación

no delictiva y que resulta hoy por hoy desde la perspectiva de las garantías y de los derechos que estoy seguro que usted comparte emprender ninguna acción disciplinaria contra una persona

de esa perspectiva podrá gustar más o menos podrá sintonizarse más o menos con los planteamientos y las dinámicas de ese colectivo pero ni es ilegal

ha citado dos casos pero no hay caso en ninguno de los dos sigamos adelante eskerrik asko erkoreka jauna

hace quince días señor erkoreka a esta misma hora cinco parlamentarios y cinco trabajadores de tubacex invitados a este pleno fueron

se iba a disolver fue disuelta violentamente creando heridas

periodistas eso está en algún manual de proporcionalidad policial

además y además lo que ha pasado por ejemplo con el uno de mayo que es mañana ya me resulta especialmente escandaloso porque usted me dirá que ha sido el tribunal superior el que impide la movilidad en el día de mañana para acudir a una movilización pero no el tribunal superior responde a un recurso de los sindicatos a una orden de su a una orden que impide la movilidad para acudir a esas manifestaciones por primera vez en lo que vamos de estado alarma si quitamos y excluimos el periodo de confinamiento están impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental y por qué se toma ahora esta decisión si se ha comprobado que los movimientos sindicales los movimientos sociales

movilizar y se puede realizar acciones de cuidado y de autocuidado como se ha hecho hasta ahora nos parece sorprendente y usted hablaba ahora

usted dice que no ha colaborado la ertzaintza en ese desalojo ilegal porque como usted bien sabe en un estado de derecho los desalojos los tiene que hacer la policía bajo orden judicial

ese edificio identificó a unos miembros de una empresa que presumían en redes sociales en ese mismo momento

en el estado español qué hacia allí la ertzaintza identificó a alguien de esa empresa

cuando se estaba produciendo un desalojo totalmente ilegal de unas personas vulnerables que estaban siendo amenazadas por una empresa fascista

a euskadi hizo algún control la ertzaintza para controlar el acceso de esos trabajadores o supuestos trabajadores de esa empresa todo esto señor erkoreka

ejemplar ya es hora señor erkoreka de tratar a los ciudadanos vulnerables a las ciudadanas vulnerables a los trabajadores y a las trabajadoras como ciudadanos de primera de tratarles como al consejero

a esa situación no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda y la ertzaintza lo tiene que respetar eskerrik asko eskerrik asko

y sin ningún carácter usted formuló una pregunta por escrito pero tenían tanta prisa en competir en el pleno de hoy que los dos la pregunta por escrito la han anticipado para traerla en el pleno y que sean los fundamentales en plantearlas aquí en el pleno la pregunta la tengo preparada ya por escrito pero bueno me ha sorprendido encontrarme con la pregunta ahora formulada para la sesión oral bueno hay una cuestión martínez que me sorprende le he hecho una afirmación contundente sobre lo que fue la participación de la ertzaintza en el asunto de abadiño ninguna relación ya entiendo que usted se resista a creerse a no aceptar las patrañas que le conviene yo acepto

sí la posverdad va por ahí que usted ha tenido un input determinado que le complace que quiere acogerse a ella

por lo que respecta a las actuaciones de la ertzaintza en relación con la policía o

ya le he dicho claramente que con el colectivo obrero o con otros colectivos actúa siempre solo exclusivamente

con derechos y libertades de terceras personas incurriendo en una infracción administrativa no hay más

igual usted y yo exactamente igual si estuviéramos cometiendo una actuación de ese tipo por tanto

ético que aparece recogido en la ley de policía aprobada en su última modificación

en esta misma cámara por lo que respecta a las manifestaciones del uno de mayo pues qué quiere que le diga la jurisprudencia está clara
y la actuación del departamento de seguridad ha sido siempre siempre la misma eskerrik asko erkoreka jauna denbora amaitu zaizu

vicelehendakari andrea como usted sabe ayer veintiocho se celebraba el día de la salud y la seguridad laboral la fecha elegida por el movimiento obrero por el movimiento sindical para recordar

en accidentes laborales y a causa de enfermedades de origen laboral pero también para denunciar las razones

no solo para denunciar las consecuencias sino también y sobre todo para denunciar el origen la raíz las razones de estas

un año entre comillas muy especial a pesar de la paralización ralentización de la economía a causa de la pandemia las cifras de

no se redujeron esto ha producido también un aumento de la ratio

al número de accidentes y nos parece una cuestión realmente preocupante por eso nos gustaría saber qué van a hacer para revertir estas malas cifras porque son

que no vuelven a casa después de una jornada de trabajo algo que no debería pasar en ningún caso eskerrik asko hernández jauna erantzuteko

no se trata de debatir solo de datos sino sobre todo y por eso ponía yo el foco en mi pregunta en las razones que están detrás de esta

tampoco se van reduciendo las muertes en accidentes de trabajo al contrario

hasta la fecha aumentan quiero decir que las políticas destinadas a acabar con esta situación con estos accidentes pues están fallando siguen fallando

hay que modificarlas hay que corregirlas hay que ampliarlas aquellas que sean las correctas la legislación en materia de salud laboral no se cumple de manera bastante generalizada en euskadi no se cumple y esto han venido denunciándolo los sindicatos en el tiempo

durante muchos años y no se cumple por una razón porque muchas empresas no se toman en serio aquellas medidas de prevención

hablar de prevención y aplicar políticas de prevención pero hace falta y eso nosotros hemos insistido muchas veces en ello hace falta más control para que las empresas cumplan

hace falta más mano dura en este sentido sí a través de inspección de trabajo y osalan desde luego usted sabe que nosotros somos partidarios creemos

y osalan pero también a través de todas las políticas del gobierno vasco que inciden en el mundo del trabajo que son en materia de empleo

pero que son transversalmente hablando casi todas las políticas que tiene que poner en marcha o que pone en marcha en su diario político el gobierno vasco porque muchas de ellas casi todas afectan al mundo

porque además de esa falta de prevención otra de las razones fundamentales que está detrás

basado en una absoluta abusividad de la subcontratación de servicios para abaratar costes en las empresas lo que genera más precariedad y a más precariedad más accidentes de trabajo por lo tanto pensamos que también las políticas que desarrollen

que está generando cada vez más precariedad en euskadi sino todas las medidas que se puedan implementar en prevención no servirán de nada frente a ese modelo que aumenta la precariedad cada día debemos cumplir el acuerdo de gobierno para acabar con la reforma laboral pero ustedes tienen competencias

mendia andrea zurea da hitza sí señor hernández bueno yo qué le voy a decir que no estamos de brazos cruzados ni en el gobierno vasco

en el ministerio de trabajo están de brazos cruzados con respecto a esta situación y es verdad los datos como le decía en euskera un muerto es ya una tragedia para todos y verdaderamente este año tenemos los mismos datos que en el dos mil veinte por lo menos de momento no estamos satisfechos y desde osalan como le decía lo que hacemos es llamar a sumar esfuerzos entre todos pero lo más provechoso yo creo es pensar también en la importante labor que está desarrollando osalan que ha desarrollado osalan en el ámbito de la salud laboral durante todo el año dos mil veinte durante todos estos años de pandemia que ha permitido que en el puesto de trabajo en euskadi los contagios sean inferiores comparativamente al resto de comunidades autónomas

con los agentes sociales y económicos elaborando esos planes para que las empresas puedan tener una menor incidencia de trabajo y tener un reinicio de actividades nos hemos centrado en este último año principalmente en las pymes porque son aquellas que menos servicios de prevención tienen más dificultades tienen en las políticas de prevención y son las que no cuentan con delegados de prevención en muchas ocasiones estoy pensando en los comercios en la hostelería

y osalan ha estado tras ellos en esta pandemia

en las pymes pero decía usted bien qué podemos hacer aquí en euskadi para mejorar la importancia de la salud laboral en la calidad del empleo y sobre todo en eso en el empleo en el gobierno vasco hemos diseñado una estrategia vasca de empleo mirando al año dos mil treinta con una vista de largo plazo y centrada en las personas y en la calidad del empleo de las personas y ahí la salud laboral es un capítulo importantísimo

vamos a tener ocasión de escuchar a todos los grupos parlamentarios van a poder hacer ustedes aportaciones enriquecer ese documento porque va a ser una estrategia que va a navegar no solo en esta legislatura sino en las dos próximas por lo tanto

euskadi cuente con una estrategia compartida por la mayor parte de las fuerzas políticas de este país y que mire a los retos del futuro que tenemos ya en nuestras puertas

la asociación de constructores europeos acaba de publicar los resultados de ventas de turismos en europa para el primer trimestre de este año y los resultados son esclarecedores

supera el millón y casi dobla a los diesel de estos de los electrificados

con una subida de venta de cincuenta y cinco por ciento mientras que las ventas de gasolina y diesel han bajado un diecinueve y veintiuno por ciento respectivamente la tendencia es imparable y los nichos de oportunidad son evidentes pero hay amenazas también el estudio conjunto

el cambio de motorización de los térmicos a los eléctricos puede suponer una reducción en alemania del veinticinco por ciento de los empleos industriales

y conocida los vehículos eléctricos tienen muchos menos componentes que los térmicos sobre todo porque el sistema de propulsión es mucho más simple y sin entrar a valorar en lo que puede suponer en términos de empleo

la automatización de procesos de fabricación avanzada etcétera así que la pregunta la pregunta no sería si será posible mantener el empleo actual

el balance de empleo neto puede ser positivo o cuando menos no negativo y resolver esta duda al menos para nuestro país

que es mucho y se hace bien o se entra de lleno en la transformación y yo creo que a medio plazo la respuesta es muy evidente

no pretende llegar a tanto digamos porque para analizar todo esto propusimos

y ni siquiera pretendemos resolver hoy muchas de las cuestiones relacionadas con la electrificación del parque móvil como la expansión de la red de recarga el fomento a la compra las capacitaciones profesionales la fiscalidad asociada etcétera hoy sí queríamos hacer hincapié en uno de los aspectos clave en el proceso de electrificación de los vehículos ligeros que está estrechamente vinculada al empleo futuro del sector de la automoción y estoy hablando cómo no de la fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos

el primero es que la batería es el alma del vehículo eléctrico y en números gruesos supone casi la mitad del peso del precio del valor

así que quien no haga baterías lo va a tener muy complicado en el futuro y el segundo motivo es que la batalla por la fabricación de las baterías de los vehículos eléctricos

hoy tanto a nivel mundial como intraeuropeo una vez que alemania y francia y sus empresas son las que traccionan han apostado claramente en europa por el vehículo eléctrico los anuncios de proyectos de instalación de factorías con capacidad

se suceden constantemente hay muchísimos proyectos pero en cualquier caso es importante poner la atención al informe que acaba de publicar esta semana el grupo suizo abb porque en él se dice que la capacidad de producción de baterías

a día de hoy la capacidad europea de producción de baterías es de sesenta

mientras el setenta y siete por ciento está en asia sin embargo europa pretende recuperar posiciones en el mercado global y hay toda una estrategia para ello

por dieciséis su capacidad de producción y llegar a un treinta y tres por ciento de la producción mundial la estrategia europea de baterías habla para dos mil veintiocho de un veinticinco por ciento cualquier caso el estudio es interesante porque nos dice que si los objetivos de implantación del vehículo eléctrico se cumplen puede no bastar con lo que se está proyectando puede haber un cuello de botella productivo nicho hay nicho es evidente y las apuestas hay que hacerlas entre ayer y hoy gure ustez

y en ese sentido yo creo que cuando hablamos de movilidad eléctrica hablamos de

hablamos del propio vehículo eléctrico cómo lo construimos cómo lo fabricamos de dónde obtenemos las materias primas sobre todo el litio y el cobalto en este momento que están ubicadas en lugares muy concretos y que desde luego no son materias primas precisamente de costo bajo ni asequible

los propios puntos de recarga en primer lugar que las redes eléctricas sean lo suficientemente perdón inteligentes

recarga importantes y después evidentemente que la red eléctrica sea sobretodo renovable porque si no estaríamos haciéndonos trampas al solitario como hemos hablado en más de una ocasión y no nos olvidemos que tenemos que introducir un elemento de reciclaje de baterías si hablamos de baterías por qué precisamente porque esas materias primas son escasas y porque son muy costosas y después hablaríamos de movilidad eléctrica en otros ámbitos si estamos hablando del vehículo

tendríamos que pasar al público tenemos que pasar al sistema ferroviario qué va a ocurrir con el transporte de larga distancia bueno son otros elementos que deberíamos trabajar y tenemos que reaccionar es cierto tenemos que mantener la actividad y al mismo tiempo reaccionar y

dónde están las principales actuaciones en primer lugar hablaba usted también política de incentivos se ha demostrado que son fundamentales para poder proceder a esa sustitución tienen que ser desde luego atractivos para qué

cantidad de vehículos como para que los podamos adquirir y que además se aumente la producción y sea a un precio asequible porque si no también estaríamos produciendo

desequilibrio social porque solamente algunas personas podrían acceder a adquirirlos en segundo lugar las regulaciones medioambientales desde luego nos ayudan en noviembre de dos mil diecisiete la comisión europea propuso

ayuda al desarrollo del vehículo eléctrico evidente pero decíamos dónde tenemos que poner el foco pues en estos momentos en el elemento más caro más complejo y desde luego que va a ser el cuello de botella como usted decía que es la parte de las baterías y eso significa que todavía tenemos que hacer un esfuerzo importante

una realidad y además considerar que además de las baterías tenemos otros dos elementos que van a ser claves que es en el desarrollo de lo que es el sistema de propulsión el powertrain del sistema y el sistema de guiado

donde precisamente nuestras empresas nuestros proveedores están muy centrados en el vehículo de combustión y tienen que hacer una transformación

algunos datos necesitamos mejorar en baterías la tecnología está mejorando como consecuencia de que todos los elementos electrónicos que utilizamos ya están usando baterías de estas características pero no a los niveles y a las dimensiones que requerimos

qué tiene que hacer euskadi y cómo lo está abordando contamos con un sistema científico tecnológico que desde luego tiene capacidades interesantes como para abordar

a día de hoy estamos trabajando cómo lo estamos haciendo a través de centros tecnológicos y empresas que están desarrollando esa gigafactoría que en nuestro caso llamamos basquevolt qué posicionamiento actual tenemos

actual sí pero sobre todo de futuro de la siguiente generación de baterías que son las baterías de litio en estado sólido que nos da toda la capacidad a través del centro cic energigune reconocido a nivel europeo como experto en esa tecnología pero todavía

a lo que es la industrialización y es lo que nos interesa acelerar en estos momentos no solamente de la mano del centro tecnológico con otros centros tecnológicos

por ejemplo cidetec que también tiene un gran conocimiento en baterías sino también de la mano de diferentes empresas y

vamos a decir bajo el liderazgo o la ayuda y la colaboración

aprender de los mejores y saber cómo utilizar la tecnología desarrollada en estado sólido a las baterías del futuro esta iniciativa no surge hoy se ha trabajado durante mucho tiempo

todavía un reto tecnológico importante pero en el que tenemos que trabajar desde el inicio hemos estado involucrados como parte de pero además hemos conseguido que otros agentes importantes de la industria vasca se impliquen en este proyecto es decir usted me preguntaba

si no llegan recursos next en este momento hay compromiso firme de varias empresas entre ellas iberdrola petronor enagas mil doscientos irizar ingeteam ormazabal

la propia cidetec evidentemente el propio gobierno y unas cuantas empresas que todavía están

también con capital no solamente para utilizarlo sino con capital para que se desarrolle este proyecto cómo nos encontramos en este momento

hay diferentes eslabones la construcción de la propia celda la electrónica de potencia lo que es el battery pack es decir ir preparándola

tenemos capacidades en todas y cada uno de los eslabones pero me gustaría señalar que lo que marca la diferencia en este caso de euskadi

en el consorcio importante es que tenemos capacidad de desarrollar celdas

en euskadi existe la capacidad de las celdas que es el elemento crítico yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos en qué punto estamos por resumir bueno trabajando en el desarrollo de ese proyecto para que se puedan ir estableciendo los siguientes pasos

de los proyectos next que deben ser gestionados por el gobierno del estado pero

estamos trabajando también a nivel europeo de forma directa en contacto con la administración del estado precisamente para que este proyecto sea considerado como uno de los relevantes precisamente por lo que le he comentado por la capacidad de construir celdas con esa tecnología de litio

relevante y de futuro que también incorpora el tema del reciclaje

al parque tecnológico de miñano en araba para poder disponer del suelo necesario para desarrollar esta actividad este proyecto en araba con el horizonte temporal necesario y trabajando insisto con innoenergy y también con la comunidad

gran relación con ellos para tener un proyecto mucho más consolidado más fuerte y con más posibilidades de futuro

de la cadena de valor es verdad sobre todo a través del cic energigune y sobre todo a través de su

tenemos una gran potencialidad porque es uno de los principales desarrolladores de las baterías de electrolito sólido

hitzak edo orentazioa ekarriz ezta en su último libro habla de la economía orientada a emisiones en el que tenemos que ponernos unas emisiones

la que planifique y la que participa también en un porcentaje

ese tiene que ser el camino porque esa va a ser la manera también de poner condiciones en cuanto a creación y consolidación y condiciones de empleo condiciones

a las empresas consorcios o lo que sea que se ponga en marcha a través de este nuevo ecosistema que se pretende impulsar a través del desarrollo

atzerapenik izan y en esta economía orientada a emisiones tenemos que contar con todo el mundo evidentemente con los centros tecnológicos con las

que no sé hasta qué punto se han metido y se lo pregunto porque es importante

que también se involucren y desde luego también lo que les animo o les exijo ya de una vez es que si nosotros creemos que el proyecto de la gigafactoría es estratégico y es importante de cara a obtener parte de los fondos europeos o el impulso ustedes también lo creen dentro de la

estatal de una vez intentemos aunar fuerzas

ignorar las propuestas que tenemos nosotros para hacer porque creemos también que podemos ser de ayuda y desde luego

a disposición de la colaboración con el gobierno para impulsar este proyecto que entendemos que es estratégico para el futuro del país la automoción el empleo etcétera

pero tenemos tecnologías que ya se están produciendo en estos momentos que ya se están trabajando tenemos oem que no solamente son mercedes que son irizar que son caf que también están utilizando baterías propias sobre todo en sus propios vehículos eléctricos en sus propios autobuses con tecnología

que también se está tratando de buscar nuevas oportunidades nuevos proyectos que también se han presentado

y desde luego en todas y cada una de ellas

dispuesto a trabajar sino que ha mostrado su interés en participar en el accionariado y en el capital de esas empresas y de esas actuaciones veremos cuántas

otra empresa nuuk que se dedica a vehículos más ligeros

tipo motos bueno también ellos están trabajando en la motorización eléctrica de todos esos elementos yo creo que tenemos posibilidades capacidades

de actuar pero desde luego tenemos que ser conscientes que en este momento como usted decía más del ochenta por ciento de las empresas vascas

por ese sistema de guiado y por el sistema de propulsión y solamente dos de ellas están en este momento haciendo una diversificación y una transformación

vamos a decir empezando a trabajar y yo creo que tenemos que ser impulsores

de que se dé la transformación de forma inmediata necesitamos además que en el momento que desaparezca el motor de combustión interna todavía va a durar un tiempo

fabricar ambos vehículos y que desde luego vayamos cambiando de un sistema a otro y prepararnos también

a la digitalización para que todo lo que sea comunicación vehículo vehículo vehículo persona vehículo carretera

vamos a decir del vehículo autónomo que entiendo que todavía por regulación no va a ser una realidad en poco tiempo

y ahí un elemento que ha hablaba usted al principio el software las capacidades de desarrollar nuevas herramientas de trabajar en la nube también en la carretera

la capacidad que vamos a tener en cuanto a gestión de datos la introducción de sistemas de inteligencia artificial yo creo que capacidades tenemos tenemos que desarrollar empresa sobre esas capacidades

es pequeña a veces inexistente y a veces pues bueno requiere también de un impulso importante es una oportunidad para impulsarlas y creo que también ahí tenemos

diversas fuerzas políticas que están en tareas de gobierno hablan sobre cambio climático pero la verdad es que hacer han hecho bastante poco al respecto

podemos ver que se ha aprobado la ley de cambio climático en el caso del gobierno vasco lleva cuarenta años elaborando muchos informes

que hablan de potenciar las energías renovables y de luchar contra el cambio climático pero

han sido planes que lo que sobre todo han hecho ha sido fomentar los hidrocarburos y que

de mucho para reducir las emisiones de ce o dos y ha sido la ley de cambio climático la que ha frenado por ejemplo la idea de este gobierno de explorar

otros así que veinte millónes de euros vayan a ser tirados a la basura

se les vaya a regalar hasta un veinticinco por ciento de los ingresos de las subastas

para que no se fuguen a países con normas climáticas que sean menos exigentes esto es lo que se llama los millónes caídos del cielo

no se vaya a euskadi a china a polonia

se van a ir de euskadi está en juego realmente el arraigo de esta empresa sin que estos millónes caídos del cielo aparezcan

es necesario acelerar las instalaciones de energía renovable y al mismo tiempo preguntaba si seríamos capaces de ir todos en la misma dirección

en principio lo que vemos son mega plantas solares y eólicas que destruyen la biodiversidad nuestros espacios naturales no sé si es esto no sé si se trata de regalar el dinero público para que se enriquezcan algunas multinacionales como pueden ser

bastante deprisa y corriendo sin concitar el consenso de los grupos parlamentarios

de los agentes sociales y de las personas de los pueblos afectados yo no sé si el partido socialista de euskadi va a acompañarles en esta apuesta o no pero

acompañar es y esta sería una pregunta que le lanzaría a la consejera

por la sociedad y la comunidad científica y que no suponga la destrucción del medio ambiente cuándo un modelo que no sea únicamente beneficioso para las grandes multinacionales y para los políticos que viven de las puertas giratorias

qué ha pasado en estos cuarenta años que parece que son cuarenta años perdidos en euskadi en el fomento de las energías renovables

por culpa de los que dicen no a todo porque realmente si alguna vez hubieran hecho proyectos de energías renovables en las ciudades aprovechando el potencial

y de los privados o de los polígonos industriales igual hubieran escuchado el sí por parte de muchos parlamentarios y muchas fuerzas políticas y sociales pero claro lo que el no se ha recibido al modelo energético defendido hasta ahora

y en estos momentos tienen también diciendo que no a los pueblos alaveses a los proyectos eólicos que se están planteando porque destruyen espacios naturales protegidos y porque generan impactos en el modo de vida de estos pueblos

la pregunta la pregunta también que le lanzo es va a aprobar el gobierno va a pasar el rodillo digamos en este asunto y aprobar

sin llegar a consensos con los grupos parlamentarios o se van a crear foros de participación para que los pueblos afectados por las megaplantas eólicas

y es que sabemos lo que ha pasado en cuarenta años y no conviene que pasemos otros tantos con malas políticas y malas gestiones

eskerrik asko presidente andrea señora gorrotxategi voy a empezar por el final porque hacer juicios de valor sin considerar

y hablar de malas políticas energéticas cuando gracias a la política energética de este país el gas ha llegado a todos y cada uno de los rincones del país

una energía mucho más contaminante como puede ser la del carbón por gas pues desde luego me parece que es cuando menos poco acertado y desde luego realista cero

uno dar continuidad a políticas que desde hace tiempo de manera voluntaria en el ámbito del medio ambiente lleva

adaptar y actualizar los mecanismos las herramientas los instrumentos legales necesarios para poder llevar a cabo este trabajo a lo largo de esta duodécima legislatura

absolutamente y rigurosamente todos los requisitos legales y medioambientales para llevar a cabo esas iniciativas no podemos hacerlo de otra manera desde luego tenemos que conseguir

en duda ni en riesgo ningún ámbito natural por supuesto que no vaya en contra de ningún informe medioambiental pero eso no lo hacemos nunca

y al abordar esa nueva política energética y de lucha contra el cambio climático en euskadi

en equilibrio no de los intereses ni de unos pocos ni de unos muchos sino en el equilibrio entre el conjunto de la sociedad de las personas que en ella vivimos y en el conjunto de todos y cada uno de los que actuamos ahí qué camino ha recorrido euskadi pues lleva bastante camino recorrido desde luego

en el dos mil dos se incorporó el cambio climático como una de las prioridades de la situación dentro de la estrategia ambiental del gobierno hace trece años

hace seis años aprobamos la estrategia de cambio climático dos mil cincuenta

que incorporaban la perspectiva climática y que organizaban todos los instrumentos de ordenación donde estaba también la estrategia energética dos mil treinta llevamos años trabajando con ambición climática qué resultados se han conseguido respecto a dos mil diecinueve

se reflejan unas emisiones de dieciocho coma seis millónes de toneladas de ce o dos equivalente

al año del dos por ciento desde el año dos mil cinco y desde luego si lo comparamos entre el dos mil diecinueve y el dos mil cinco llegamos a un veintisiete por ciento de reducción en el dos mil cinco se emitieron veinticinco coma cinco millónes

de gei dieciocho coma seis millónes en el dos mil diecinueve

nuestra evolución en la huella ecológica también se ha visto reducida en un siete por ciento desde el año dos mil uno llevamos años trabajando en economía circular desde el año dos mil la economía vasca ha crecido un veintiséis por ciento mientras que el consumo de materiales se ha reducido un veinticinco por ciento

datos euskadi está reconocida como una de las regiones más activas en la unión europea en la acción contra el cambio climático

en su informe del año dos mil veinte nos ubica en la posición dieciocho de las regiones del mundo

existe un compromiso político claro y desde luego con el lehendakari a la cabeza en el año dos mil diecinueve en julio del dos mil diecinueve se declaró la emergencia climática

objetivos desde luego para la legislatura diez objetivos y alguno de los cuales desde luego está relacionada con reducir las emisiones de efecto invernadero

la reducción y los vamos a revisar al alza como consecuencia de lo que se ha aprobado en la unión europea recientemente y además

y este objetivo no lo vamos a lograr únicamente con la instalación de

necesitamos más energía renovable y desde luego con una tecnología no de hace cuarenta años o con la tecnología local

de autoconsumo y de consumo comunitario de todo

tiene suficiente con instalación de pequeños paneles solares seamos realistas y voy

y que desde luego hemos trabajado mucho con la ministra teresa rivera para conseguir que todas las comunidades autónomas seamos conscientes del reto al que tenemos que hacer frente

de emisiones de gases de efecto invernadero para el año dos mil treinta aparece que tenemos que reducir al menos un veintitrés por ciento respecto a lo que emitíamos en el noventa pero además tenemos que generar el setenta y cuatro por ciento de electricidad con renovables hoy es dos mil veintiuno para el dos mil treinta creo que nos queda un camino un poquito

insisto con paneles solares solamente en nuestros tejados este objetivo es imposible la propia ministra nos conmina a todas las comunidades autónomas a que pongamos en marcha también proyectos importantes para conseguir ese objetivo y además hablamos de eficiencia energética

pero es que si vamos al dos mil cincuenta tenemos que llegar a un cien por ciento de energía renovable en el sistema eléctrico el señor otero se ríe porque sabe perfectamente que eso

voy a decirlo como muy difícil no lo voy a poner en imposible pero muy difícil desde luego sí por tanto nos tenemos que poner yo creo en serio a trabajar este tema en serio con un programa marco ambiental programa de bioeconomía de economía circular y bioeconomía de tal manera que nuestros bosques nos sirvan por una parte para ser sumideros de ce o dos y por otra parte para utilizar la celulosa la madera la celulosa proveniente de la madera para sustituir

creo que es un elemento crucial tener una ley de administración ambiental que ya está registrada en esta cámara y que tenemos que sacar adelante

con la elaboración de la ley de transición energética y cambio climático también en marcha y que desde luego provoquemos una transición que sea

eso es lo que nos tenemos que poner como objetivo y desde luego desde el punto de vista de controles ambientales con todas las garantías insisto y con todos los controles desde luego cuando se va a establecer sea un parque eólico sea un parque fotovoltaico

de todos los informes de impacto ambiental de autorizaciones ambientales integradas de autorizaciones y todas las licencias municipales necesarias

perdón de todo el plan de ordenación del territorio se pueden asumir y en el caso de eólico tenemos un pts vigente y estamos trabajando en un nuevo pts con todas las garantías

la actividad humana y el cuidado del medio ambiente y el cuidado de los espacios naturales y repito algo que dije hace ya unas semanas hablando de este tema cuando la propia europa define por ejemplo la red natura dos mil y todos los cec

lo que habla es que tenemos que hacer compatible la actividad económica y la actividad humana con la preservación de la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente y el cuidado de esos espacios naturales y tenemos que hacerlo compatible ese es el objetivo

hacerlo compatible en todos y cada uno de los aspectos y desde luego

de esos parques eólicos esos parques fotovoltaicos de una dimensión mayor se harán de esa manera sin olvidar el objetivo de la eficiencia energética y sin olvidar que los proyectos pequeños comunitarios y de utilización desde luego placas solares o pequeñas instalaciones de biomasa o de otro tipo de energías renovables van a ser imprescindibles para también desarrollar

eskerrik asko mahaiburu andrea berriz ere me habla de la dificultad para lograr los objetivos en estos años claro es que por eso le decía es que porque dónde hemos estado en los últimos cuarenta años ese es el tema

de que el gas ha llegado a todos los hogares si la apuesta por el gas del gobierno vasco es conocida pero y qué pasa con el resto de las energías renovables que son las que ahora nos hacen falta

durante todos estos años y en cuanto a la reducción de las emisiones

o simplemente con que se han cerrado muchas industrias que resultaban ser contaminantes

hablaba de otro tipo de plantas eólicas precisamente como sustitutivas de no solamente se trata de pequeños paneles solares

en relación con este proyecto eólico hemos presentado alegaciones a los parques eólicos en los montes de iturrieta de arkamo y de labraza

de los pueblos pero también también y nuevamente voy a hablar de la ley de cambio climático porque en

y puede pasar ahora con estos proyectos klima aldaketaren

de energías renovables se garantice la participación ciudadana y es algo que hasta ahora

es algo que están también reivindicando asociaciones como por ejemplo arabako mendiak

algo a tener en cuenta por otra parte sigue

que parece ser que sí o sí van a ser subvencionados con fondos europeos y si no con fondos vascos es decir van a ser doscientos veinte millónes de fondos sean europeos o vascos

la cuestión es sin ningún tipo de condición a estas empresas se va a sufragar con dinero público un proyecto que no reduce las emisiones globales

pero no sé si lo es tanto para la lucha contra el cambio climático este proyecto ya

en dos mil veinte con la petrolera saudi aramco y claro si le sale gratis con fondos sean europeos o vascos pues ya el negocio va a ser buenísimo pero hay que tener en cuenta que

verde no para producir energía sino para mezclarlo con el ce o dos capturado en las chimeneas y para producir combustible sintético al capturar estas emisiones

cuando ese combustible sintético fuera combustionado en coches o aviones entonces sí se emitiría ce o dos es decir es una manera de externalizar las emisiones lo cual supone

en la reducción de emisiones globales cero esto es

el ahorro de los costes de mercado derechos de emisiones de ce o dos alrededor de cuarenta y nueve euros por tonelada porque no emitirían el ce o dos al capturarlo y además estos derechos de emisión se podrían vender obteniendo también millónes con ello es decir es un gran pelotazo

precisamente para saber si son actividades que se pueden establecer o no en caso de que existan daños que se puedan de alguna forma revertir revertirlos y si son irrecuperables no proceder con el proyecto por tanto no estoy descubriendo nada

sin más el nuevo plan territorial sectorial de energías renovables en este momento se ha empezado ya con la tramitación y le tengo que asegurar

el avance y el estudio inicial están ya desarrollados y ya están en marcha en el proceso de participación ciudadana que comenzamos ya

para finales de verano esperamos que la primera fase se haya terminado y estemos en la segunda fase de participación ciudadana que va a culminar con la interpretación y la contestación a todas y cada una de las alegaciones que se presenten

la semana pasada se inició ya se ha puesto dentro de la plataforma todo el proyecto para recabar la participación ciudadana y en segundo lugar en los próximos días ya a partir de la próxima semana se trabaja con tres

uno por cada territorio histórico en el cual vamos a tratar de aunar diferentes agentes departamentos y entidades del gobierno vasco y de diputaciones forales y ayuntamientos asociaciones de todas las características organizaciones empresariales y sindicales empresas del sector energético vasco universidades y todo el ámbito de investigación e innovación científica diferentes clúster colegios profesionales y personas expertas todos estos van a estar

a partir de la próxima semana pero la nueva política energética de euskadi pretende tener una visión más amplia un enfoque

de manera que los retos y objetivos sean asumidos en el conjunto de la planificación que realizamos además tenemos herramientas que van a estar incluidas dentro de cada uno de los planes que tenemos que elaborar y que se están elaborando el pcti elaborado ya

prácticamente finalizado y que se presentará en esta cámara espero que antes de verano el plan de economía circular y bioecomomía dos mil veinte perdón

el plan de residuos dos mil treinta la estrategia de transformación digital

todas las actuaciones que vamos a llevar a cabo van a tener incorporado la visión de cambio climático y la visión de energía cómo lo vamos a hacer con respeto y con responsabilidad

europeo tratando de fomentar una economía sostenible una economía justa donde todo lo relacionado con la lucha contra el cambio climático

y generar riqueza al mismo tiempo que conseguimos los objetivos mencionados es nuestra apuesta es nuestra apuesta por trabajar de forma conjunta y con todos los agentes que estén dispuestos a hacerlo

pero desde luego con los objetivos que se marcan desde la propia unión europea tratando de compaginar todos los intereses los económicos los ambientales y los sociales eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señorías miembros del gobierno señor azpiazu don pedro maría le interpelo hoy señor azpiazu

en la que se está gestionando todo lo que es el proceso planificador relativo a los fondos europeos y también una cuestión muy importante que va a ser la forma de implementación o las consecuencias que puede tener

y también en defensa de nuestras competencias autonómicas y forales

de las necesarias reformas que va a ser obligatorio implementar para acceder a estos fondos

el tema de los fondos europeos se ha discutido en este parlamento tuvimos un pleno monográfico efectivamente pero como ha sido habitual a lo largo de todo este proceso que ha sido

no sé cómo decirlo casi casi de camarote de los hermanos marx perdone que rebaje un poco el lenguaje pero yo creo que en esto coincidirá usted conmigo que esto ha sido un poco

por usted no por su equipo ni mucho menos en esto además estoy aquí otro viernes más para solidarizarme incluso empatizar con la posición que usted tiene en todo este proceso digo que esto ha sido un poco un desorden absoluto en una cosa que es muy seria porque el tema de los fondos europeos va a suponer

de las generaciones que ahora vivimos aquí pero también del futuro de las generaciones por eso la forma en la que se ha gestionado todo esto me parece un poco despropósito es que esto se ha parecido a un espectáculo quizá en línea con lo que le gusta al presidente del gobierno que ha llegado a presentar el plan sin especificarlo demasiado siete u ocho veces

le voy a hacer dos tipos de consideraciones unas relativas a lo que ha sido la gestión del proceso en sí

un poco por su parte que se podría haber hecho mejor y finalmente lo relativo a la situación en la que nos encontramos y cómo nos va a afectar el necesario

que va a ser obligatorio llevar a cabo si queremos tener acceso a esta financiación en cuanto a lo primero lo que ha sido todo este proceso digamos de no sé si negociación o planificación sería el término técnico pues mire en primer lugar llama la atención el auténtico desfase

los dos planes el plan nacional españa puede finalmente y

insisto esto no es responsabilidad suya directamente porque claro aquí lo que ha pasado es que evidentemente el gobierno vasco solo tenía una parte de la información cuando hizo su planificación el plan españa puede está compuesto por diez políticos que son treinta componentes y luego ciento diez inversiones claro

en que el gobierno vasco hizo la planificación es verdad que se podían haber actualizado pero claro ya pues hombre no sé yo si incluso habían prometido algunas inversiones entiendo que políticamente les resultaba a ustedes ya complicado

etcétera distintos muchas veces de los definidos por españa puede de los que cuelgan las distintas propuestas en segundo lugar

ánimo de meterme con demasiado detalle porque consumiríamos todo el tiempo de esta interpelación pero hombre el problema principal que se observa aquí es que las iniciativas del programa euskadi next del nuestro siguen siendo

de generalidad creo que en algunos aspectos son demasiado generales entiendo por qué es posible que lo hayan hecho entiendo que esto no es un error de principiante sino que entiendo que han podido hacerlas generales

gestión con fondos europeos es decir a la comisión europea a las agencias europeas

acaban invalidando los procesos y acaban evitando que lleguen nuevas subvenciones con lo cual los apaños que muchas veces se hacen a nivel interno en el ámbito nacional

que debemos tener en cuenta en tercer lugar falta en nuestra opinión y creo que la oposición también en términos generales puede creo que mantiene

esta opinión falta yo creo o ha faltado siempre debate en la definición de los proyectos ha faltado de las ciento ochenta y siete iniciativas me puede corregir si me equivoco que se incluyen en el programa euskadi next pues no se han debatido en este parlamento tuvimos un pleno monográfico eso sí pero tuvimos un pleno para establecer

en el que ahí podían entrar a concurso distintas opciones distintos proyectos la excusa o el argumento bueno es que había que buscar proyectos rápidos tractores etcétera claro pero eso se puede arbitrar

el gobierno español está haciendo ahora con ustedes lo mismo que ustedes hicieron aquí con la oposición que es

qué oportuno se está mandando o parece que se manda ese libro que lleva el presidente del gobierno que nadie ha visto abierto

y nosotros tampoco de eso hemos visto nada la falta de debate la definición de proyectos

y esto si usted estuviera en el otro lado porque de hecho lo estuvo en su momento lo censuraría igualmente otro argumento hay una falta

las cantidades qué va a pasar hombre evidentemente entiendo que dirán bueno pues intentaremos compensar los proyectos que creamos más importantes con fondos propios etcétera ya pero cómo de qué manera cómo decidimos lo va a decidir otra vez el gobierno vamos a hacer una comisión de expertos insisto

lo que es fundamental cuando se trata con dinero público europeo es el tema de garantizar una auténtica transparencia y competitividad entre todas las opciones posibles pero claro si me dicen no pues competirán entre los proyectos que ya ahí pero hombre ya ha operado usted un cierre de mercado

pero bueno además de todo esto existen desajustes en las iniciativas que se han presentado muchas veces por componente pero esto también tiene que ver

pues claro con esa total descoordinación que ha habido insisto que no se la achaco directamente a usted hay una parte que sí pero evidentemente esto dependía de que si el gobierno no les dio toda la información desde el principio y esto ha ido evolucionando entonces querían también correr para presentar ante este parlamento un proyecto rápidamente pues es lo que ha pasado y en estas cosas

vamos a tener o vamos a sufrir las consecuencias al final todos a lo mejor no estamos ya ni usted ni yo aquí pero

y luego como consecuencia de todo esto señor azpiazu de estos anteriores llamémoslo errores asimetrías descoordinaciones en la planificación

dos problemas que además yo creo que son dos problemas casi casi permanentes

en primer lugar hay sectores olvidados hay sectores olvidados si hubiéramos tenido a lo mejor un debate en profundidad sobre el tipo de proyectos hubiéramos tenido una comisión que con luz y taquígrafos hubiera establecido unas prioridades a la hora de adjudicar los proyectos

alguna cuestión que queda olvidada el sector aeronáutico directamente quizá indirectamente de algún proyecto que sí pero directamente es cierto que por ejemplo el sector aeronáutico o por ejemplo hay iniciativas también

y que de repente ahora que parece que hay dinero se saca no como el caso del puerto de mutriku que usted conocerá bien no que se lleva desde el dos mil dieciocho presupuestando la cantidad

no se ejecuta y ahora se fía a que se ejecute con fondos europeos no que por cierto han previsto librar subvenciones hasta el año dos mil veinticuatro entiendo que eso sean fondos propios porque si son fondos europeos tendremos un problema porque esto hay que cerrarlo como usted bien sabe

en todo caso esto es la parte digamos censurable de la parte planificadora que entiendo que aquí coincidirá conmigo al menos en algunos aspectos

y luego los aspectos quizá más jurídicos más que jurídicos

que la gobernanza del plan lo cierto es que la gobernanza el plan deja mucho que desear en todo su proceso y luego el segundo punto

una cuestión relativa a que parece ser que va a haber que tocar el tema de las pensiones el mercado laboral la administración pública

lo hemos analizado detenidamente y aquí está suprimir el tema de la bonificación a los hidrocarburos o sea que

eso está aquí eh eso está aquí en el programa del gobierno central

porque estoy preocupado por las competencias autonómicas porque todo esto va a afectar a las competencias autonómicas y forales hoy señor azpiazu porque claro todas estas reformas hay que implementarlas en el ámbito también de nuestras competencias propias

cuáles son sus propósitos a este respecto o sencillamente mirándonos a los ojos

españa ha enviado su plan nacional de recuperación transformación y resiliencia a bruselas hemos podido leer en los medios de comunicación

además de los setenta mil millónes de subvenciones que tiene cuatro pilares transversales transición verde

cohesión social y territorial e igualdad de género y que las inversiones implementarán en los próximos tres años hemos escuchado también que la ejecución del plan permitirá sumar al crecimiento del pib dos puntos porcentuales de media

en mi opinión una lluvia de cifras que aún no ha llegado a tierra que aún no ha cuajado

pero no es la primera vez que muestro nuestra profunda preocupación por la fórmula que se está eligiendo desde el gobierno de españa para el diseño de este plan

y del que todos los gobiernos debemos ser partícipes que es lo que procede en un estado de las autonomías y porque además

la pagaremos entre todos y entre todas comparto también con usted que no se tiene noticia

porque efectivamente no ha sido consensuado tiene más parecido con un modelo de encomienda de gestión que como comprenderá no podemos compartir y menos en competencias propias usted sabe que hemos trasladado al gobierno español nuestra queja por la forma

que dicho sea de paso no incluye proyectos concretos sino ámbitos de actuación y partidas presupuestarias profundizaré más adelante sobre esta cuestión

nos preocupa además la obsesión por la recuperación rápida y que se pierda la oportunidad de transformar de verdad nuestra economía es decir que nos preocupa que la mirada del gobierno de españa esté puesta en el veintitrés y no por ejemplo el año dos mil treinta

que permite la unión europea es decir el año dos mil veintiséis y esta no es una cuestión baladí la obligación de ejecutar los setenta mil millónes de subvenciones en dos mil veintitrés que plantea el estado español pone

europa condiciona su entrega al cumplimiento como usted dice de hitos y objetivos que con los plazos que se manejan va a ser muy difícil si no imposible de realizar

y nos veremos perjudicados por ello los años sucesivos

este planteamiento supone le diré que euskadi es la comunidad autónoma más eficiente en el gasto del estado

y en euskadi hemos ejecutado el noventa y ocho coma nueve por ciento del presupuesto la administración general y organismos autónomos la media del estado es del noventa y cuatro coma sesenta y cuatro la segunda comunidad sería cataluña con el noventa y seis coma ochenta y uno esto en lo referente al presupuesto ordinario

usted me plantea además en su interpelación sobre las medidas que el gobierno vasco implementará para acceder a esos fondos y entiendo que para canalizarlos verá

está perfectamente identificada y recogida en la ley de presupuestos de euskadi para el año dos mil veintiuno es más para poder organizar nuestros mecanismos de gobernanza y afrontar de esta manera el reto que va a suponer la gestión de los fondos

este gobierno ha creado una viceconsejería de economía y fondos europeos

de la programación seguimiento y evaluación de los fondos feder del react y del mrr entendemos que es muy necesario que existan sinergias en el uso y la gestión de todos fondos procedentes de europa

unión europea está promoviendo para optimizar su utilización además hemos creado una comisión interdepartamental en la que tienen voz

que se encuentran trabajando de forma bilateral y participando en las conferencias sectoriales con el gobierno español asimismo la ley de presupuestos contempla que el gobierno comparecerá cada tres meses para dar cuenta de los avances que puedan darse cuando los haya evidentemente

para finales de mayo de forma que todos ustedes puedan estar bien informados de los pasos que se han dado y de los frutos de un intenso trabajo que estamos realizando por lo tanto

no puede ser de otra manera ante un reto de este calibre como le comentaba me gustaría profundizar en algunas cuestiones porque creo que todos los partidos aquí presentes debemos aunar esfuerzos

de este ambicioso proceso a pesar de la ausencia de solicitudes de información y de consultas a las

en el marco de la elaboración del plan españa puede contraviniendo así

este gobierno ejerciendo su responsabilidad y yo diría que sin que nadie se lo pidiese elaboró

un ejercicio de responsabilidad como le digo pero muchas de las políticas públicas relacionadas con la recuperación

son competencia como bien sabe del gobierno vasco en segundo lugar de recuperación transformación y resiliencia de españa no es necesario que se sepa que el mismo no lleva ningún proyecto

son líneas de inversión y reformas que dan forma a treinta componentes que contienen

incluye partidas presupuestarias para componente que luego hay que aterrizar concretar planificar y ejecutar en los plazos comprometidos con europa por cierto con respecto a los mecanismos de gobernanza establecidos por el gobierno de españa

pero parece que de momento esta se ha reducido al ámbito de la implementación

de las cuantías distribuidas en distintas ventanillas a través de los ministerios a través de las conferencias sectoriales vamos descubriendo a modo de cuenta gotas las líneas de inversión y transferencias que en su caso le correspondían al país vasco líneas de inversión para cuyo diseño no se ha tenido en cuenta el nivel desigual de desarrollo de las políticas públicas

por su mejor posición relativa una decisión que merma la posibilidad de emplear las fortalezas del país como palancas para la recuperación la transformación y la resiliencia en efecto la distribución de recursos entre ministerios y el reparto posterior que estos están realizando hacia las comunidades autónomas

debilidades en lugar de reforzar las fortalezas

están perfectamente alineados con el plan nacional tal y como el propio gobierno español ha manifestado públicamente en más de una ocasión poniendo

como ejemplo de buen hacer en nuestro programa usted mismo puede ver cómo se ha buscado la integración estando nuestros componentes definidos en clave de retos homogéneos que es necesario abordar

en euskadi next no hay ningún proyecto que no pueda encajar en al menos una componente

para que se haga una idea no hay más que ver cómo han funcionado las manifestaciones de interés lanzadas desde los diferentes ministerios para darse cuenta de que la fragmentación a la que ha abocado la estructura del plan españa puede ha provocado que un mismo proyecto

partes del mismo a distintas manifestaciones de interés en definitiva señor gordillo esto no ha hecho sino

va a ser una carrera de fondo y falta mucha información por conocer nosotros apostamos por un uso de los fondos volcados en la transformación que traerá la recuperación

por sus respuestas y por que reconozca la evidencia que es la situación en la que estamos lo que usted ha dicho es muy grave es decir

lo ha dicho se ha enterado por la prensa de que el gobierno español

la carta o el documento con la reforma sin haberlo consensuado en segundo lugar

de comunicación interna y sobre todo pues con toda esta hiperobsesión por hacerlo todo rapidísimo en dos tres años

y luego la justificación patada hacia adelante le tocará a otro gobierno pues esto es muy grave señor azpiazu

pues que no repitamos los errores que están repitiendo en el ámbito nacional y por eso saludo la comparecencia que ha anunciado en la comisión que me toca a mí presidir y saludo también que vaya a venir aquí a dar explicaciones nosotros también le seguiremos interpelando sobre esta cuestión porque la consideramos capital

incluya expertos de verdad expertos de verdad por favor

que incluyera por lo menos para estar informados directamente porque son cuestiones técnicas también personas que pudieran designar los grupos parlamentarios que componen esta cámara eso ayudaría mucho en todo el proceso de transparencia porque es cierto que es una cuestión muy técnica pero hombre yo creo que los grupos parlamentarios tienen capacidad de designar

de lo que insisto es la oportunidad que tenemos de una reconstrucción realmente duradera y sensata para las próximas generaciones

y con el presidente es el presidente que han puesto ustedes señor azpiazu con lo cual

es decir italia pues se hace un consenso también con las regiones y se hace un programa realmente teniendo en cuenta todos los actores e incluso también al sector privado a través del public private

y se presenta un plan serio diciendo además que va a haber que hacer reformas dolorosas

el bienestar a largo plazo y eso es lo que no se está haciendo en españa y yo por eso le pido que

esos errores estaremos vigilantes y para eso va a tener nuestra cooperación como le llevo diciendo desde el inicio de la legislatura mire en el tema de las reformas que son necesarias porque van a ser necesarias para acceder a estos fondos europeos

pues hombre esto toca de lleno competencias que son autonómicas permítame que lo desarrolle brevísimamente es que esto toca competencias autonómicas cuando nos referimos a políticas laborales porque estas inversiones en lugar de estar dirigidas directamente o solamente a pagar ladrillo o a cubrir

alguna otra ausencia presupuestaria lo que hay que hacer es invertir en personas hay que invertir en personas en capacitación eso es lo que va a garantizar

va a haber que reformar la administración pública estamos ahora en este parlamento vasco analizando y gestionando vamos en el proceso de aprobación

hombre digo yo que una incidencia ahí pues tiene que haber se han mandado compromisos se dice va a haber compromisos y de reformas en materia de política fiscal además se pone política fiscal verde y tal que insisto es lo del diesel

en el caso que se toque la fiscalidad hay que tener en cuenta a las diputaciones forales también

que el gobierno nacional ha realizado por su cuenta realizado por su cuenta y riesgo sin tener en cuenta las comunidades autónomas por eso nosotros vamos a estar vigilantes pero le pido también señor azpiazu que

porque esta situación de verdad es que no se puede sostener le reitero nuestra mano tendida

ganas de colaborar realmente pero una colaboración sincera para que todo este proceso realmente revierta en el bienestar

creo que estamos en ello de forma constante y con ánimo constructivo el gobierno vasco presentará

y esperemos que todas estas cuestiones sean modificadas al menos en gran parte llevamos meses definiendo con los agentes e instituciones implicadas e incluso hemos podido analizar detalladamente las aportaciones realizadas por los grupos de la oposición

algunas cuestiones que son claves para afrontar este colosal reto y que se encuentran recogidas en el reglamento del mecanismo de recuperación

un mercado interior europeo que funcione correctamente para lograr un crecimiento justo integrador y sostenible y contribuir a la creación de empleo esta propuesta fue enviada por el lehendakari al presidente de gobierno el señor sánchez hace más o menos un año

de la unión europea los fondos no deben ser para cubrir gastos ordinarios en tercer lugar a las autoridades regionales y locales se les debe hacer partícipes y consultar debidamente

hasta su implementación seguimiento y control y desde nuestro punto de vista en aras a asentar la transformación necesaria

las acciones previstas deben aprovechar las estrategias de especialización inteligentes avaladas además por europa en el marco de la política regional mostrando paradójicamente una mayor sensibilidad por la misma que la que ha tenido hasta el momento el estado español como saben euskadi

especializado en salud personalizada energías

desde luego son ámbitos que nos permitirían competir globalmente y enlazo con esta cuestión para adelantarles a todas y ustedes que

incluye una figura que vamos a proponer al gobierno de españa de cara

no nos veamos obligadas a trocear proyectos estratégicos multisectoriales y plurianuales los ámbitos tractores regionales

si es que esa figura del perte logra concretarse más allá de las vaguedades que conocemos hasta la fecha esta figura busca aprovechar

como palanca sobre las cuales sostener e impulsar la transformación

desde el marco financiero plurianual de la comisión europea dos mil catorce dos mil

impulso en el ámbito de la política de cohesión y del uso de los fondos estructurales

principalmente a través del pcti dos mil veinte y recientemente renovada

está plenamente alineada con la doble transformación que se pretende

esta figura refuerza la complementariedad y coherencia en el uso de los distintos fondos europeos

que el gran reto es ser capaces de apostar por la transformación ya que orientará la recuperación con un mayor efecto multiplicador

en la inmediatez le invito a poner todo de su parte en esta gran aventura indeseada

porque es nuestra responsabilidad se lo debemos a esta generación y a las generaciones futuras

dos mil veintiuno dos mil veintiséis supuso un hito en el diseño respuesta colectiva al desafío de afrontar la era postcovid desde el convencimiento de que el regreso a la normalidad previa ni es deseable ni es viable ni es factible

con la clave transversal de la igualdad en todas las políticas vamos a poner el foco también en verificar

en la trascendencia de evaluar y monitorizar el impacto de género en cada uno de los proyectos donde se invierta este dinero

de que es un compromiso personal de este gobierno y de los partidos que le sustentan le animo una vez más a usted y a todos los grupos de la cámara

por delante porque creemos que fracasar no es una opción eskerrik asko eskerrik asko

zurea da hitza gracias señora presidenta señor consejero a la vista de la difícil situación que está pasando el aeropuerto de san sebastián
me veo en la obligación de preguntarle de nuevo sobre esta infraestructura estratégica para gipuzkoa

en octubre del año pasado ustedes me respondieron a una pregunta por escrito sobre este mismo tema que lo único que estaban haciendo para este aeropuerto era nombrar a los representantes

esta sociedad fantasma perfecto modelo de chiringuito

sin que se vea ningún resultado el veinticinco de marzo de este mismo año

entre otros firmaron ustedes una pnl en el congreso también la firmamos nosotros en el congreso de los diputados que

en colaboración con aena la operatividad del aeropuerto su conectividad y la recuperación del tráfico aéreo

ustedes se comprometieron a continuar con las inversiones necesarias para mejorar los servicios y la seguridad de las operaciones pero como usted sabe el aeropuerto

actualmente solo tiene un avión un vuelo de iberia a madrid a mediodía que además arroja pérdidas para iberia

completamente inadecuados y se escuchan voces incluso que anuncian el recorte de dicho vuelo

la situación por tanto es un tanto límite y hasta el punto de que en una extraña interpretación de la normativa anticovid

continuamente cerradas a los pasajeros hasta una hora antes de los vuelos obligando

el aeropuerto de san sebastián necesita muchas cosas pero sobre todo necesita una buena gestión e inversiones

y luego se siga jugando al juego de siempre dejar que se muera para trasladar todo el negocio a bilbao o a biarritz por eso hoy le pregunto señor consejero qué actuaciones ha llevado a cabo su gobierno con aena para abordar las inversiones necesarias en el aeropuerto de san sebastián desde el inicio de la legislatura

gracias señora presidenta señor gil conoce usted perfectamente

sino que participa junto con la diputación de gipuzkoa la cámara de comercio y los ayuntamientos de donostia san sebastián

para el desarrollo y funciones de promoción económica de este aeropuerto es en este marco en el que se establece la interlocución habitual con aena

aeropuerto así como de su ejecución en los últimos meses y teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que nos encontramos los encuentros se han realizado de forma telemática y telefónica tanto con enaire la entidad pública gestora de la navegación aérea en españa como con aena

presidenta pues la verdad es que si lo que están haciendo para

en fin como ejemplo de la situación actual le daré solamente algunos datos la base de operaciones

y hombre preocuparnos por el aeropuerto en general sí que debería ser su responsabilidad

porque no hay vuelos y todo su personal está en proceso de traslado a otros aeropuertos pero le voy a dar otro dato todavía más sangrante el treinta y uno de marzo de este mismo año

su consejería ha concedido a la sociedad promotora del aeropuerto de foronda una subvención por la jugosa cifra de tres millónes de euros

de que es necesaria y de que seguramente es conveniente pero por qué no

en un aeropuerto como el de hondarribia que lo necesita tanto o más y que le podría salvar perfectamente eso sí antes habría que reestructurar

para que empezase a funcionar de verdad o buscar otra vía para que ese dinero se emplease de verdad en recuperar

con las compañías aéreas y con las autoridades competentes en la ejecución de las inversiones pero este ejercicio dos mil veintiuno aena y enaire

la ampliación de la plataforma de giro de los aviones y la implantación del sistema de aproximación

ha sufrido una cierta demora como consecuencia de la suspensión durante el estado de alarma o de los procedimientos administrativos necesarios para poder ejecutarlo y en estos momentos aena

por parte de costas por su parte el sistema automático de aproximación por satélite

lo que entre otras cuestiones ayudará a reducir el número de desvíos a otros aeropuertos cercanos haciendo a su vez más atractiva la infraestructura aeroportuaria

y debido a la cercanía de este aeropuerto con francia está llevando a cabo la necesaria coordinación del proyecto con el proveedor del servicio de navegación aérea francés la previsión del aire es que este sistema

ambas actuaciones van a suponer una mejora de la seguridad y operatividad del aeropuerto a corto plazo

de la pandemia y sus afecciones a la movilidad seguimos trabajando para que recupere vuelos y capte nuevas rutas en consecuencia

con su planteamiento en la exposición un poco apocalíptico a partir de junio se van a incrementar las frecuencias de los vuelos con destino a madrid pasando de catorce vuelos semanales a veinte

con catorce vuelos semanales incrementen estas frecuencias a partir de julio a veintiocho

además ya es conocido se publica hoy en el diario vasco que este verano el aeropuerto va a ofertar dos rutas nuevas con vuelos a palma de mallorca y menorca entre finales de junio

y seguiremos trabajando para lograr nuevos destinos tanto nacionales como extranjeros aunque evidentemente todas estas previsiones están vinculadas a las restricciones de movilidad y su evolución y seguimos abiertos como departamento a posibilidades que puedan plantearse por el resto de socios de ortzibia como en su caso

por los socios de vía para poder implementar otras acciones de promoción eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamaseigarren puntua

de lo que puede llegar a ser el tav en euskadi o de lo que ha venido siendo

a vueltas y doce años de casi llega

señor arriola qué opinión le merece a usted la llegada del tav al país vasco eskerrik asko larrea andrea arriola jauna zurea da hitza gracias señora presidenta señora larrea le reconozco
que hace una redacción tan abierta a su pregunta y una exposición tan abierta

lo que le puedo decir es que la llegada del tren de alta velocidad a euskadi es un proyecto que se está ejecutando en sus distintos tramos muchos de ellos finalizados otros bastante avanzados y otros ciertamente con más demora de lo que nos gustaría pero

es el compromiso del gobierno vasco y del departamento que dirijo

aun siendo una infraestructura de titularidad estatal este gobierno está ejecutando a través de encomienda de gestión buena parte de las obras en concreto la práctica totalidad

y aspiramos a ejecutar también parte de los accesos a bilbao y a vitoria gasteiz

lo haga posible eskerrik asko arriola jauna larrea andrea zurea da hitza miren no pongo en duda en ningún momento

ni de usted mismo pero mire sabe lo que pasa que los gobiernos o sea aun siendo

del gobierno de la nación no siendo competencia de este gobierno aquí hay que luchar vale por la llegada del tav y claro en todos los gobiernos sustentados por el pnv por el partido socialista unos con otros otros con unos pues

no ha sido que venga al tav aquí al país vasco de hecho

con el partido nacionalista vasco pues son beneficiosos para el partido nacionalista vasco pero no para los vascos

veo las declaraciones que hace usted en la prensa cuando nos dice que ya

bueno que no sabe que los proyectos se han hecho con el corazón

con la técnica y habrá que poner la voluntad que es lo que ha faltado mire le voy a recordar que en el año dos mil dieciséis vino aquí el ministro de fomento íñigo de la serna fue a bilbao le recibieron como un rey

y él tenía un proyecto un calendario y unas fechas de licitación

yo me genera mis dudas si en estos acuerdos entre medias entre gobiernos unos gobiernos con otros hemos salido perdiendo los vascos

la llegada de la alta velocidad no es solo una querencia de unos pocos sino que traería muchos beneficios a la sociedad vasca beneficios económicos

un abanico de posibilidades entonces me gustaría saber cuál es el futuro que queremos realmente para euskadi nosotros lo que pedimos es una calendarización que precise para cuándo se licitará el proyecto para cuándo terminará el proceso de estudio informativo

de este gobierno vaya a madrid y negocie esos términos y negocien esos términos por qué porque en un momento dado tendremos que sacarle los colores al gobierno de la nación para decirle ustedes no han cumplido con sus objetivos

objetivos que los vascos tanto necesitan y de verdad necesitamos saber

la alta velocidad a bilbao cuándo va a llegar a vitoria cuándo va a llegar a san sebastián y todo esto es en beneficio de todos los vascos no pongo en duda

central y mire tan importante es el corazón la técnica como la voluntad y

a los ciudadanos de vitoria que hoy sí hay soterramiento que mañana no hay soterramiento tenemos que tener certezas los ciudadanos vascos tienen que tener certezas qué es lo que quieren los gobiernos qué es lo que quieren los gobernantes para ellos

de usted consejero no solo una opinión técnica sino una opinión de saber cuál es la voluntad real para negociar donde haya que negociar la llegada del tav a euskadi gracias

de extraordinaria complejidad sin embargo hace una lectura de la situación partidaria porque es evidente que su objetivo fundamental es al gobierno socialista de españa y de paso también al gobierno vasco por cierto habla usted

de declaraciones desafortunadas imagino que de este consejero

ministra de fomento del partido popular que en dos mil quince siendo ese año el de menor inversión

anunció que a este ritmo de inversión el tav estaría acabado en euskadi en dos mil diecinueve pues vaya

que en noviembre del dieciséis se comprometió a dar un impulso determinante del proyecto

por parte del gobierno de españa y en dos mil diecisiete la inversión no solo no aumentó

he dicho siempre que para llevar adelante obras de esta envergadura hacen falta decisión voluntad política esfuerzo inversor y tiempo y no hay nada más gráfico que observar el volumen de inversiones a lo largo del tiempo para comprobar

y quién no en los últimos cuatro años del gobierno socialista

esto es entre dos mil ocho y dos mil once el gobierno de españa invirtió en esta infraestructura más de setecientos sesenta y nueve millónes de euros por el contrario en los cuatro últimos años del partido popular y rajoy al frente entre dos mil quince y dos mil dieciocho

millónes de euros a partir de dos mil diecinueve la inversión vuelve a una tendencia ascendente

lo que nos dicen estos datos es que para que avance la inversión necesaria para acometer las obras y las soluciones en la y vasca lo mejor

es que siga habiendo un gobierno en españa presidido por el partido socialista por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la tuya

cómo puedes decir a tu hermano hermano deja que te saque la paja del ojo

hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja

señor fernandez de betoño lo que yo creo y yo he dicho en muchas ocasiones ya

está siendo muy compleja y eso unido a otros condicionantes que ya he explicado en más ocasiones ha hecho que no se hayan podido acertar en los plazos que se han ido

a lo largo de los años y es un hecho como ya he expuesto en la respuesta que acabo de dar a la señora larrea que ha habido periodos de tiempo en los que ha existido

por parte del gobierno de españa impulso que casualmente ha coincidido con las presidencias socialistas no hay más que ver

ha sido mucho más limitado eskerrik asko

en mi primera comparecencia en esta legislatura dije entre otras cuestiones que iba a reunirme con el gobierno de españa

y poder concretar unos plazos realistas de ejecución teniendo en cuenta el estado en que se encuentran las actuaciones pendientes y los presupuestos disponibles en la actual coyuntura

que al margen de las integraciones urbanas en bilbao y vitoria se sitúa a finales de dos mil veintiséis o inicios de dos mil veintisiete y lo volví a decir públicamente el pasado viernes

también dije que en el desarrollo del tav ha habido muchas vicisitudes entre ellas el ataque de eta y esto

más que la constatación de una realidad ha suscitado estos días un debate que ha llevado incluso a algunos de ustedes a analizar el triste

no todas las dificultades se pueden atribuir a eta evidentemente pero tampoco se puede restar gravedad a lo que pasó durante años los terroristas amenazaron y extorsionaron a las personas y empresas relacionadas con el tren de alta velocidad

asesinaron al empresario inaxio uria esto es un hecho

fuimos capaces de poner en marcha la primera encomienda de gestión del ramal guipuzcoano en su conjunto licitando y adjudicando todos sus tramos

y dije en dos mil once que las obras de la plataforma ferroviaria en el ramal guipuzcoano podían estar acabadas a final de dos mil dieciséis pero tampoco crea usted que me equivoqué tanto

todos los tramos de la encomienda de gestión en la primera encomienda de gestión están finalizados desde hace años

todavía en ejecución ya que el contrato de la obra se tuvo que rescindir en el año dos mil diecisiete debido

funcional del tramo establecido por adif por otra parte las obras de las estaciones de ezkio y atotxa incluidas en la segunda encomienda

a la solución de los accesos e integraciones del tav

cuyos estudios informativos se encuentran en fase de tramitación ambiental una fase larga y compleja que compete al gobierno de españa pero no tenga la menor duda de que desde el gobierno vasco intervendremos cuando el desarrollo de los trabajos lo haga posible porque esta es una infraestructura esencial para euskadi

y sostenible con el resto de españa y con europa y aunque a ustedes les pese

ukaezinak bihurtu si algo nos ha dejado esta pandemia son experiencias totalmente políticas y lo he dicho aquí muchas veces son políticas las vivencias de las personas que han estado en la primera línea de los cuidados las trabajadoras de las residencias que seguían desbordadas

falta de material de protección la falta de manos o la angustia

las de quienes se vieron encerrados en esas residencias de los que vivieron sus últimos días solos solas sin que nadie les agarrara fuerte de la mano o quienes tenían a sus familiares allí o de los que han perdido a su ama a su aita sin poder despedirse sin saber

recuerdo el testimonio de un familiar de una de las personas residentes en una residencia de bizkaia que manifestaba sentirse horrorizada horrorizada

y que no había refuerzo alguno para atender lo que allí estaba pasando

herri duin batek ezin du horrelakorik onartu este fin de semana mi amigo felix arrieta escribía un artículo muy interesante en el que decía que este año ha puesto patas arriba los cimientos de nuestros conocimientos

sailburua por fin por fin se tiene que rendir ante la realidad señora artolazabal

garrantzitsuegia da le diré señora artolazabal que cuando leí sus declaraciones y lo hice con mucha atención

en torno a un tema con la idea según señalaban de poder avanzar hacia un sistema más individualizado y humanista para decirnos en la siguiente frase que el proceso servirá para revisar o no el modelo actual tiene su aquel es por lo menos curioso prozesuaren helburua da eredua nola hobetu baina hausnarketa gidari izan behar du

y no puedo entender que se inicie un proceso de reflexión desde ahí pero es muy significativo a mí me da señora artolazabal que usted sabe que no le queda más remedio que tiene que hacer algo

nuestro modelo de cuidados señora artolazabal es un modelo escaso que en los últimos años ha ido reduciendo de manera notable

cada vez más la ciudadanía tiene que buscarse la vida cuando les surgen las necesidades de cuidado

que no es otra forma que de fomentar la privatización de los servicios sociales

y eso no es aceptable y no es cuestión de sostenibilidad es cuestión de derechos agian horregatik agian ez seguruenik prozesuak

aceptables no es una cuestión de exigencia señora artolazabal es una cuestión de derechos y a usted como consejera de políticas sociales le toca garantizarlos y en ese sentido también echamos en falta en ese grupo de

hay cada vez personas más dependientes que no pueden decir lo que quieren zaintza duinak nahi dituzte nola zainduak izan nahi duten erabakitzeko eskubidea izatea

y lo reconocía la enfermera gerontologa que le acompañó en la presentación

en el que la toma de decisiones era ajena a la persona usuaria y en el que primaba el café para todas el papel lo sostiene todo pero la realidad señora artolazabal es muy tozuda

también presenta zainlab un proyecto para contribuir a generar

profesionalizado en el área de los cuidados a las personas mayores otro proceso participativo amplio que permitirá contar con experiencias piloto de un modelo preventivo personalizado comunitario que nos va a permitir también una actuación integral entre los servicios sociales sanitarios políticas de vivienda

que ahí ustedes han andado un poquito cada una por su lado cuando es imprescindible cuando es más necesaria esta reflexión

veo que no hay nadie al volante o que cada uno anda como pollo sin cabeza horregatik artolazabal andrea jakin nahiko nuke nola burutuko den hausnarketa prozesu hori

la pandemia ha situado a nuestra sociedad en un mundo y en un contexto en el que por una situación inédita desconocida e imprevisible

formas de trabajo necesariamente colaborativas también dinámicas de trabajo coordinado con las que ya veníamos realizándolo pero que se han visto reforzadas en este momento de crisis dar respuesta coordinada incrementando la intensidad de mecanismos y herramientas de colaboración con las que ya contamos de manera estructural

coordinada tanto desde la urgencia como

es un compromiso clave lo abordamos en un marco más amplio en el que estamos trabajando un marco de cuidados sociales y en ese amplio marco abogamos por un modelo propio de cuidados que igual no coincide con el suyo

reconocer reducir redistribuir los cuidados y representar las necesidades de las personas cuidadoras en situación de exclusión este modelo vasco debe preservar también la contribución a los cuidados de los cuatro sectores de la sociedad las familias y comunidades

nuestras empresas y también el sector público por tanto

estos son elementos básicos en la construcción de un marco de trabajo en el ámbito de los cuidados sociales elementos básicos desde la coordinación interdepartamental e interinstitucional y este planteamiento parte desde la constatación de que somos personas las que cuidamos a las personas pero también conformamos sociedades e instituciones responsables

responsables de desplegar un sistema de cuidados sociales sanitarios educativos orientados al bien común sistemas de cuidados orientados a asegurar espacios de protección

al margen de su situación contribución o estatus el contexto social que afrontamos reclama que reorganicemos socialmente los cuidados que los

que los valoremos y que también lo repartamos y esta es una tarea que debe ser compartida por hombres y mujeres por las instituciones públicas por las familias o la comunidad

todo esto desde planteamientos teóricos y prácticos que quedará recogido en la política de cuidados sociales que en breve presentaremos esta política persigue reforzar los cuidados institucionales de las personas a lo largo de la vida y en particular de las más jóvenes y mayores y de qué manera

que representa el cuidado familiar respecto al institucional impulsando los servicios y funciones de responsabilidad pública incluido el apoyo a las familias y profesionales cuidadores y fortaleciendo la atención primaria y secundaria en la comunidad por otra parte y como usted bien señala señora kortajarena también desde otros departamentos del gobierno

y estamos coordinados así el departamento de empleo y trabajo

un proyecto de construcción de una estrategia de empleo y emprendimiento para esos cuidados de comunidad zainlab sería una oportunidad para emplear a muchas personas que no encuentran trabajo o que lo han perdido en otros sectores

cooperación desarrollada ya en legislaturas anteriores entre empleo lanbide políticas sociales y educación todas estas medidas se complementan entre sí ya que parten de un objetivo común trataremos de dotar de un mayor reconocimiento social y salarial

buena parte de ellas migrantes reconocimiento a través de formación específica y habilitaciones para desarrollar su trabajo con mayores garantías la dirección de servicios sociales del gobierno ha realizado más de diez mil habilitaciones a quienes trabajan a personas con dependencias así como en categorías profesionales de cuidadoras y gerocultoras elementu horiek hasi dugun hausnarketa baten parte dira

diguna estamos haciendo una reflexión a través de agenda nagusi

y después de esa reflexión después de los resultados de esa reflexión modificaremos si fuera necesario si es necesario el modelo y el decreto que tenemos puesto en marcha que nace

parlamentario aprobado en esta cámara y lo compartiremos también con la mesa de diálogo civil de euskadi con las redes y asociaciones de mayores vinculadas a la misma esta vía representa también un conjunto de oportunidades para quienes envejecen en euskadi y que puedan tomar parte y compartir la definición de los problemas que les afectan buscamos que puedan colaborar con la administración en la búsqueda de soluciones con la más amplia base posible este proceso participativo

y posible reorientación del actual decreto de centros residenciales para personas mayores proyecto de decreto que en todo caso como siempre lo trabajaremos en el ois con las diputaciones forales y eudel

pretendemos recoger el conocimiento la opinión la experiencia de un número de personas importantes relacionadas con las residencias incluyendo la perspectiva de persona usuaria destinataria también desde el punto de vista profesional incluidas las mujeres profesionales que trabajan en estos ámbitos

en los entornos familiares sociales empresariales y políticos se desarrollarán foros específicos con la ciudadanía en general

y también organizaremos encuentros con las instituciones públicas con los profesionales del sector con los colegios profesionales con los sindicatos y con los partidos políticos asociaciones de personas mayores y entidades del tercer sector social por tanto señora kortajarena toda aquella persona que tenga algo que decir en este ámbito

va a ser consultada para que pueda dar su opinión además hemos puesto en marcha paneles con personas expertas del ámbito académico relacionado con el envejecimiento y la calidad de vida

como puede comprobar un amplio abanico de puntos de vista que permitirá reflexionar sobre si nuestro modelo es válido

qué dificultades y oportunidades ofrece o qué otros modelos son posibles las conclusiones de este proceso nos permitirán actuar en consecuencia tanto en lo que haga referencia

como a la atención y el concepto de residencia y los cuidados en general hacia las personas mayores todo este proceso de reflexión se llevará a cabo durante el año dos mil veintiuno en el que también hemos trabajado y vamos a trabajar en la mesa de diálogo social ya que está abordando expresamente contenidos relacionados con la igualdad señora kortajarena y también con la política de cuidados por otro lado desde el compromiso de mejorar todo aquello que esté en nuestras manos creo que también es necesario poner en valor las mejoras que el decreto

trajo con su aprobación avances que supusieron garantizar a las personas usuarias los cuidados y la asistencia personal necesaria

asegurar que las personas usuarias mantengan sus relaciones y su participación en el entorno comunitario y favorecer su sentimiento de seguridad hay que recordar que veníamos en el pasado de una visión más paternalista eso es cierto

este decreto impulsó la evolución hacia un modelo de atención residencial más comunitario y centrado en la persona y en sus capacidades y este decreto que está actualmente en vigor ha sido muy útil durante los difíciles meses de esta pandemia

y este decreto en vigor se ajusta también a los criterios de calidad establecidos

y de la calidad de los servicios sociales para terminar como ya le señalé en anteriores comparecencias este es un contexto de envejecimiento progresivo y en el que debemos seguir trabajando

bonanzas que ha traído ese decreto si eso es así y si ha sido de tanta importancia en la gestión de esta pandemia cosa que dudo porque

que estaban establecidos vinculados a las condiciones materiales y funcionales recogidas en el decreto no eran de aplicación porque contemplaba un periodo de carencia

no sé cómo han podido determinar esta situación es evidente que la situación de la covid

tensionaría cualquier sistema de cuidados pero como

la cuestión es que el nuestro no ha aguantado ni el primer asalto señora artolazabal

ante esa situación a mí me sigue sorprendiendo que se inicie un proceso de reflexión de las características que usted nos ha planteado aquí coordinado ya

que cuando uno no sabe muy bien qué decir dice dos cosas una que coordina y otra que incorpora los elementos como de manera transversal

muchas dudas el que todavía no se baje usted del guindo y reconozca que el modelo

y usted lo decía en la presentación en teoría el modelo tiene una orientación y otra cosa es la práctica y otra cosa es la práctica porque la gerontóloga que le acompañó no hablaba de que el modelo era paternalista antes del decreto el modelo

dagokizu la situación ha reafirmado esta pandemia ha reafirmado

señalaba ya hace mucho tiempo y es que tenemos un modelo vasco de cuidados que resuelve los cuidados de manera escasa

y mercantil y que externaliza las responsabilidades de cuidados

de las funciones que le correspondían por ejemplo en la inspección las consecuencias las hemos sufrido estos últimos meses de la manera más brutal señora artolazabal la vulneración de los derechos de las personas que necesitan cuidados y sus familiares

ninguna vulneración mayor al derecho de los servicios sociales como se ha dado en esta pandemia

libremente los cuidados unos cuidados que ofrecen cada vez menos calidad menos dignidad y sobre todo menos felicidad y tranquilidad vital y las precarias condiciones de las trabajadoras del ámbito de los cuidados no personas mujeres que hacen un trabajo que es verdaderamente esencial

toca parar y reparar y situar los cuidados en el centro del debate político y pese a quien pese esto es inaplazable toca resignificar los cuidados urge repensar cómo queremos ser cuidadas cómo queremos cuidar y sobre todo cómo y en qué condiciones queremos que nos cuiden

como usted ha terminado su intervención hay cosas

cuando ustedes siempre dicen que el decreto no está en vigor y periodo de cadencia

estaba únicamente referido a lo que eran las infraestructuras no tenía nada que ver

y publicado en el boletín el nueve de septiembre y el lehendakari lo ha dicho hoy en esta tribuna que euskadi es la comunidad autónoma que

siendo un número muy importante creo que ese también es un dato que hay que tener en cuenta por tanto es verdad que es necesario revisar y en eso estamos y es verdad que si fuera necesario después de las conclusiones de esa revisión cambiaremos lo que haya que cambiar en el decreto y en lo que tengamos que cambiar

nueve coma cinco por ciento de la población de euskadi representaba o tenía alguna limitación ligada a un problema de salud o a su edad avanzada y para completar esta visión se estimaba que entre sesenta mil y ochenta y dos mil personas familiares eran cuidadoras

y con el objetivo de asegurar esas condiciones para que esas personas mayores que así lo deseen y están en condiciones de hacerlo puedan seguir residiendo en su domicilio porque esa también es una parte muy importante de los cuidados porque el número de personas que van a las residencias

todo ello enlazado con quienes deseen cuidar y seguir cuidando también a sus familiares en una situación de dependencia de discapacidad con una enfermedad crónica

en el caso de que las personas por una u otra razón pasen a vivir en un recurso residencial

todo este planteamiento de atención a las políticas que envejecen unido a las necesidades de cuidado reproductivo nos sitúan en un marco de análisis y reflexión en el que se enmarca nuestra política de cuidados sociales

comunes para todos y todas basados en el respeto de las competencias la coordinación la colaboración interdepartamental e interinstitucional

es y quiere ser una política centrada en el cuidado social una política amplia

de las personas mayores una política que integra la perspectiva de género de origen con los principios de equidad y diversidad una política transversal e interconectada con otros agentes con otros departamentos y una política de inversión social y conectada con el reto demográfico quisiera añadirle que en ese marco colaborativo orientado a impulsar políticas de transición hacia un nuevo modelo de cuidados basado en la democratización de los mismos

cuidadoras dignificar y reconocer socialmente los cuidados y redistribuirlos reduciendo la proporción

son dos ejes clave de esta estrategia reforzar el cuidado institucional y promover la implicación

transformando la asignación social de roles en función del género y esto es fundamental

y quisiera terminar incidiendo en el modelo de cuidados que queremos desarrollar

también queremos que las personas que quieran trabajar o que quieran cuidar de sus personas queridas puedan hacerlo y que son opciones personales que tenemos que respetar que además son elementos valiosísimos que no podemos perder como sociedad promoviendo eso sí un cuidado familiar

y que es cuidada critico corresponsable y conciliable y me gustaría concluir recordando que los servicios sociales de responsabilidad pública

sino desde la colaboración público social o público

una aportación privada diversa que incluye muchas residencias gestionadas por cooperativas por entidades sociales por empresas sociales y por otras empresas el decreto

a todos los centros y usted como bien sabe es necesario tenerlo eskerrik asko artolazabal andrea

legebiltzarkideok hay cifras y cuestiones que consiguen ser centro de la atención mediática y otras que no la vacunación los contagios o la incidencia del virus son nuestro pan de cada día y es importante saberlas

pero para comprender más profundamente todo necesitamos también otras cifras

no las tenemos cifras invisibilizadas y ocultas u ocultadas algunos ejemplos

o cuántas plazas hay disponibles para personas que están en la calle o cómo está la lista de espera de los servicios sociales

ni siquiera se conoce salvo a toro pasado los desahucios que están pendientes de ejecución o los que vendrán tampoco se llega a conocer el tiempo que una persona puede estar

mientras muchas estamos pendientes de cuándo podremos movernos de un municipio a otro o cuándo podremos volver a la vida normal hay otras señora artolazabal

lo que les preocupa es su vida los derechos no se los arrebataron el día que se declaró el estado de alarma su vida es un permanente estado de alarma

y esto esto sí que es grave la vulneración de sus derechos empieza cuando se les obliga a estar en una situación administrativa irregular

empieza cuando la única fecha que somos capaces de asegurarles es la de la fecha de salida del albergue o del recurso de urgencia en el que están y sabe una cosa que esto deviene en muerte fátima

son los nombres de las personas que en el último año han muerto en la calle en euskadi han muerto en la calle es que a mí se me ponen los pelos de punta

qué está pasando hablemos de más cosas tenemos encima de la mesa la ley covid

creemos que hace falta bueno que falta contenido

nada sobre alternativas habitacionales asegurar con toques de queda vigentes y por eso también le interpelamos hoy a usted

que se ha vendido como la estrategia covid para la atención del sinhogarismo donde sin el tercer sector la atención a mil personas que atienden al día no hubiera sido posible hemos conocido su inclusión en el presupuesto para este año entendemos o sobreentendemos que es que es algo que ha venido para quedarse pero hasta cuándo dura lehen urratsa hasta cuándo tiene previsto continuar y

le hacemos esta pregunta porque si atendemos a la cifra de desalojos que se prevén

que el que prohíbe los desahucios si seguimos con una política migratoria que prima el control sobre el derecho a migrar si seguimos creyendo que lo peor ya ha pasado

pues vamos a permanecer ciegas a la ola que ha ido creciendo tras la primera segunda tercera y cuarta ola y que se llama la ola de la exclusión

va a venir como consecuencia de la destrucción de empleo de las dificultades para acceder a una vivienda de la saturación de los servicios sociales y que es obligación nuestra y suya y que es una obligación por ley a hacer efectivos

y queremos saber queremos saber qué va a hacer el gobierno vasco para abordar el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas en riesgo de exclusión social eskerrik asko

agradezco su pregunta y compartimos las preocupaciones zurekin bat nator

la estrategia vasca para personas sin hogar dos mil dieciocho dos mil veintiuno es un instrumento adecuado para mejorar el sistema de atención al sinhogarismo y no solo desde los servicios sociales además de desarrollar un enfoque basado en la vivienda debemos impulsar una división preventiva centrada en la prevención de la exclusión residencial grave y con una intervención temprana se trata de contribuir con esta doble vía a la atención y a la prevención a la reducción del número de personas sin hogar

ha tenido un efecto evidente en el sinhogarismo pero hemos tratado de convertirla en una oportunidad los efectos de la misma junto con la gravedad de la situación que afrontan tiene un impacto directo en la salud y en la esperanza de vida de estas personas es por eso que es necesario seguir trabajando para reducir al máximo el sinhogarismo y atender directamente las situaciones

esta es la base de la estrategia de personas sin hogar esta estrategia además de los objetivos ya señalados de prevenir y reducir el sinhogarismo se basa en una planificación centrada en la persona y en la vivienda se trata de una estrategia integral que aborda

está orientada a la mejora de la calidad de los servicios que se prestan en alojamientos temporales y de acogida diurna y nocturna

y garantiza el adecuado desarrollo de la cartera y el mapa de servicios sociales un aspecto importante relacionado con la elaboración de esta estrategia y que considero de vital importancia es el hecho de que los ejes objetivos y directrices que la conforman han sido elaboradas y consensuadas por un grupo de trabajo interinstitucional creado a tal efecto

esta estrategia y su desarrollo está más presente en nuestra actuación desde marzo del año pasado la pandemia nos hizo reaccionar en muchas áreas

el de la atención a las personas sin hogar ha sido también una preocupación

el confinamiento decretado al inicio de la pandemia y la decisión del gobierno de españa de cerrar pensiones y hoteles dejaron en la calle a centenares de personas

muchas medidas tienen sus pros y sus contras y la decisión del gobierno español de cerrar aquellos recursos en aquellos momentos tuvo indeseadas consecuencias sociales

incrementando de manera preocupante el número de personas que se encontraban en situación de calle

nos encontramos entonces ante una realidad crítica y que requería una atención de urgencia

gracias a la experiencia y trabajo previo de la colaboración que venimos realizando desde el gobierno junto con el resto de administraciones públicas y entidades del tercer sector social

en el marco de la mesa de diálogo civil activamos la comisión de exclusión con el objetivo de atender y colaborar con dichas entidades en la atención a todos esos colectivos que quedaban en calle sin recursos en soledad

y como no podía ser de otra manera en colaboración con ayuntamientos con diputaciones forales y con otros departamentos del gobierno como vivienda y salud creamos

que nos permitió diseñar ocho programas para llegar a centenares de personas con nombres y apellidos

personas con proyectos de vida y anhelos de futuro que no debían verse truncados por la pandemia

eran las personas que estaban en calle o que se habían quedado en calle y a las que había que darle solución inmediata de alojamiento y cobertura de las necesidades básicas entre otras cosas

a personas sin hogar aterpeak fue el programa que durante el confinamiento habilitaba lugares para acoger a personas en situación de sinhogarismo en las tres capitales

la vigencia de este programa ha estado vinculada al confinamiento

supone una última red para cobertura de las necesidades básicas de personas o familias con falta de recursos que no pueden acceder a las aes ni a la rgi en dos mil veinte se repartieron

erdu se trata de un programa de intervención en proximidad de adicciones que atendió el año pasado a ochocientos treinta y dos personas muchas de ellas personas sin hogar que estaban en recursos habitacionales por el confinamiento y lehen urratsa que usted mencionaba que incorpora la puesta en marcha de itinerarios desde los recursos de alojamiento y acogimiento y acompañamiento social de las personas sin hogar

durante el confinamiento durante el año dos mil veinte las ocho entidades que intervienen en el programa

estamos convencidos de que estos programas creados en un momento de crisis nos han ofrecido la oportunidad de conocer mejor al colectivo identificar de manera personalizada las necesidades que hay que atender y ofrecer alternativas de alojamiento a personas que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad la crisis puede generar necesidades y problemas pero debemos tener también la capacidad de poder identificar oportunidades que nos generan las crisis

hemos podido aprovechar gracias a esta labor conjunta estas oportunidades el confinamiento nos permitió identificar una a una con nombres y apellidos

o casi todas se encontraban atendidos en los dispositivos de aterpeak finalizado el confinamiento a todas insisto a todas las personas acogidas

y el acceso a una prestación para cubrir necesidades básicas a través de azken

casi setecientos personas aceptaran la oportunidad que se les ofrecía y en estos momentos están siendo atendidas

estamos orgullosos de haber evitado que centenares de personas cayeran en la exclusión más extrema volviendo a la calle

ahora pueden hacerlo en pensiones o albergues abriendo nuevas posibilidades de integración

para que conozca de primera mano el trabajo que están realizando esta

está permitiendo a las personas atendidas engancharse a un proceso más continuado con las entidades sociales toda esta actuación está en conocimiento

están siendo intensificadas en los últimos meses y se están incorporando a la estrategia de personas sin hogar y en cuanto a lo que vamos a hacer a partir de ahora señora gonzález de manera extraordinaria le diré que en el año veintiuno vamos a mantener los programas diseñados en el año dos mil veinte para seguir atendiendo aspectos habitacionales como de cobertura de necesidades básicas o atención a adicciones muy enfocados a las personas sin hogar con casi nueve millónes de euros

estamos en permanente contacto con las entidades sociales escuchamos sus preocupaciones y también su satisfacción por los avances de los últimos meses

la necesaria actualización de la ley de extranjería para disminuir el sinhogarismo facilitando la regularización de la situación administrativa de las personas migrantes para que puedan optar a un contrato

puede ser clave para remover las dificultades que eviten el éxito de los procesos de integración y provocan situación de exclusión y sinhogarismo y conocedora de sus preocupaciones
estoy segura de que va a influir en la misma dirección que viene haciéndolo este gobierno eskerrik asko artolazabal andrea

artolazabal sailburua siempre hemos dicho que sobre el papel quedaba muy bien la estrategia y esos proyectos esos programas que ha mencionado tomo nota de esos contactos que me dice pero realmente yo le quería poner un ejemplo

nosotras dijimos que nos parecía abocada al fracaso y el ejemplo de bilbao por ejemplo en septiembre había cuatrocientos noventa y cuatro

más doscientos veintitrés en la calle las plazas ofertadas en aquel momento por el ayuntamiento gobierno vasco más las especiales que se habilitaron por la ola de frío eran seiscientos treinta y seis es decir que no se llegaba a cubrir el máximo número para las personas que eran demandantes y

que está en la calle y sabe lo que pasa que igual no estamos

o igual no estamos llegando como no le estamos prestando la atención que se merece no es algo con lo que convivir cuando pasamos por la puerta de el corte inglés o delante de un cajero

sinhogarismo es estar sin hogar y cuando alguien no tiene hogar es porque la institución no se lo está proveyendo porque lo de tener casa va de la mano intrínsecamente de tener dinero así que la vida es para

el capitalismo puro y duro y claro no le voy a decir yo que usted sea la máxima responsable del mismo

el tema del capitalismo no le parecerá mal pero sí le voy a decir que ustedes pueden hacer políticas que mejoren la vida

la inhumanidad del neoliberalismo políticas por la vida frente a políticas que alimentan la muerte

pues se puede decidir no hacer políticas por la vida de quién pues se pueden igual por los directivos de iberdrola o de

y entonces eso quiere decir a veces que unas vidas importan más que otras y por eso por eso

que necesita esos recursos de urgencia y no le voy a decir que esas vidas no les importen porque eso sería demagógico por mi parte le voy a decir que no están reparando en ellas

que no están dialogando con ellas puede ser

también puede ser por aporofobia por la fobia a la pobreza y esto es duro y es muy duro y cuando tenemos responsabilidad institucional en esta situación ya vemos que lo del sinhogarismo no es un proceso espontáneo no es

lo que estamos haciendo es necropolítica es política con la muerte sin que se alimente la vida y que le estoy diciendo que sus políticas matan de facto

lo que le digo es que la necropolítica es dejar morir crear políticas en las que se van muriendo poco a poco

prefiero ser efectiva porque a mí la vida de quienes no tienen hogar

abordemos de una forma efectiva y transversal mirémosla con honestidad con humildad y hagamos buenas políticas y unas propuestas pues un servicio de coordinación que el pez grande no se coma al chico que las políticas lleguen a todas a todos los municipios

hacer efectivo el empadronamiento social a que traten a la población en riesgo de exclusión social como ciudadanía que son el derecho a la salud y a una vacunación efectiva

y que hay que ir pensando qué va a pasar cuando decaigan los erte cómo vamos a afrontar unos niveles de pobreza extrema y bueno y que nos pongamos a ello que vamos a apostar por una empatía radical

por el blindaje de los derechos y por darle a los servicios sociales el carácter digno que deben tener

gonzález de todas las cuestiones que le he ido planteando ya veníamos trabajando con este colectivo de personas

complejo que tiene una realidad muy diversa y que era necesario

que sí que pudo hacer resurgir una situación especial para estas personas porque había algunas sí que se encontraban en calle pero otras siguieron abocadas por decisiones políticas que les expulsaron de los lugares o de los alojamientos en los que vivían pernoctando

nosotros hemos intentado dar solución en una situación urgente

lo hemos hecho de la mano de esas entidades del tercer sector y de verdad cuando yo comparto las reflexiones y cuando compacto el trabajo con ellas y con las personas que han sido las beneficiarias había una que decía que estaba muy agradecida que se hubiera puesto en marcha esta serie de iniciativas un usuario una persona que había recepcionado las ayudas porque por primera vez se habían acordado de ella permítame que le subraye la encomiable labor que realizan

peñascal las comisiones anti sida bizkaisida y sida álava

etorkintza fundación jeiki y decenas de otras entidades sociales

la exclusión social y el sinhogarismo a todas las personas que se les atendió durante la época de la pandemia

se les dio una alternativa a todas una alternativa habitacional

una pequeña ayuda que les permitiera salir de esa situación tan compleja y eso nos ha permitido identificarlas además que confíen en nosotros

ir trabajando en ese itinerario de inclusión en una sociedad como es la que tenemos nosotros en este momento diseñada y eso es un paso muy importante y que nos da una satisfacción para poder seguir trabajando

están en una vía de salir de esta situación de exclusión es difícil articular una única causa para verse en una situación tan dramática y las intervenciones han de articularse primero en el plano preventivo para evitar que caiga en esta situación pero luego debemos

y es significativo que no todas las personas aceptaran la oportunidad de acceder a ese recurso habitacional que le decía señora gonzález algunas porque ya iniciada la actividad económica contaban con recursos propios y otras porque no quisieron

de menores y de jóvenes en situación de vulnerabilidad porque también es un colectivo muy importante

desde los proyectos singulares de lanbide buscando avanzar desde la cooperación interinstitucional

por la pandemia y el fin de la legislatura pero nuestro objetivo es volver a activar la puesta en marcha de un proyecto más ambicioso incorporando

los programas del fondo se han cumplido quince meses desde el inicio de la pandemia hemos dedicado

a los colectivos más desfavorecidos a familias monoparentales con menores a cargo a jóvenes migrantes a personas con problemas de salud mental

a trabajadoras del hogar sin papeles ni contratos a mujeres en el entorno de la prostitución a la infancia en riesgo de exclusión

y estamos ahora a punto de finalizar la vigencia de la actual estrategia vasca de personas sin hogar y tenemos la oportunidad de incorporar todo este aprendizaje a la siguiente estrategia

con las que pretendemos ofrecer un lugar de encuentro para reflexionar sobre el impacto de la nueva situación sociosanitaria en la realidad de las personas sin hogar

reorientación durante los próximos años contamos con una ventana de oportunidad que se ha abierto y puede tener un recorrido más allá de la pandemia

y queremos valorar su estandarización y su consolidación tenemos que seguir dando oportunidades a estas personas que le importan a usted tanto

erabakiari buruz barrio jauna zurea da hitza sí gracias presidenta buenos días

consejera señorías interpelamos hace dos semanas al gobierno para que amarrara la

y no lo hicieron gran decepción para nuestro grupo parlamentario señor zupiria la uefa comunicó hace unos días a las instituciones vascas su decisión de apartar a bilbao del conjunto de sedes

dos mil veinte por no asegurar una serie de condiciones solicitadas por la entidad deportiva las instituciones vascas usted entre ellas

han anunciado posibles acciones jurídicas contra la decisión

las condiciones y sin embargo arremeten contra las instituciones deportivas que tenían un planteamiento normal en esa situación

por qué sí en tantas ciudades europeas y no en bilbao la hemos transformado en cómo valora la decisión de la uefa de retirar a bilbao como sede

presidente andrea señor barrio le voy a expresar la valoración del gobierno vasco haciendo referencia a la carta que enviamos a los ministros de cultura y salud

y con otra referencia extraída de una respuesta de la ministra de sanidad también anterior

enviamos el pasado dieciocho de diciembre dos días después de la interpelación que usted me planteó en esta cámara a

textualmente lo siguiente los responsables institucionales vascos no estamos dispuestos a asegurar a las federaciones europea y española de fútbol compromisos que a día de hoy son imposibles de prever ni mucho menos anteponer objetivos de otro tenor

y a la garantía del cumplimiento de las condiciones de comportamiento y convivencia social que a día de hoy se han demostrado como las únicas eficaces para impedir la transmisión de la enfermedad y su contagio la uefa en nota de prensa que hizo pública

comunicó que los cuatro partidos previstos inicialmente en bilbao se trasladarían al estadio de la cartuja en sevilla añadía la celebración de estos partidos cuenta con el apoyo de la comunidad autónoma de andalucía

al treinta por ciento de la capacidad del estadio y apostillaba por lo tanto

estos partidos a otra sede en ese país anfitrión simplemente subrayó

después de un año sin volver a ver el fútbol en directo en los estadios y terminaba esta decisión permitirá un ambiente festivo en todos los partidos que se celebren en la competición de selecciones más importante de la uefa

en una carta que recibimos después de la comunicación de uefa nos decía textualmente

las circunstancias sanitarias y la necesidad de proteger tanto a deportistas como a los ciudadanos asistentes impiden el desarrollo normal de estos eventos

han sido de uso público el gobierno central lo que aconsejó al gobierno vasco fue que fuera más flexible en las condiciones para

fuentes del ministerio de cultura pero eso es lo que aconsejó más flexibilidad

las instituciones vascas pero qué han hecho roma

es decir por qué no ha habido conflicto

nosotros hemos visto que la uefa la federación española de fútbol y el gobierno de españa no han entendido la actitud

que el gobierno de españa pidió flexibilidad en relación con las condiciones además hemos

hablar de motivaciones políticas qué motivaciones políticas

no entendemos esa acusación ha sido una gran decepción señor

algo ha fallado en la posición de las instituciones vascas y el tiempo para más

poniendo condiciones de imposible cumplimiento no se fueron preparando para los escenarios de público que va a haber que ir organizando es decir era una oportunidad para hacer bien las cosas era una oportunidad para hacer bien las cosas y que el mundo viera que hacíamos bien las cosas

la han perdido ese es el elemento esencial de todo esto hay sistemas hoy en día de protección de la seguridad y de la salud aforos reducidos como iba a tener que ser que son compatibles

que son compatibles con la cultura como espectáculo eso se podía haber ido poniendo en marcha desde luego para el beneficio que eso iba a causar y no hubo un planteamiento propositivo en ese sentido sino negativo y de descarte y eso fue unilateral por su parte luego

pero fue unilateral por parte de las instituciones vascas no les pareció mal que fueran personas de bilbao y de san sebastián a sevilla a las finales de la copa

lo cierto es que es lo que ha pasado una gran decepción un perjuicio económico comercial y de imagen

zurea da hitza señor barrio

del ministerio de salud es la que le he leído que dice que por el momento las circunstancias sanitarias y la necesidad de proteger a deportistas como a ciudadanos impiden el desarrollo normal impiden la presencia de público la uefa ha retirado la candidatura de dublín

no han querido asumir ningún compromiso de presencia de público

se ha comprometido a tener presencia de público ese mismo día por la tarde

habló en su nombre y en nombre del departamento de salud del gobierno de baviera diciendo que no habían asumido ningún compromiso sobre la presencia de público

de cultura ha asegurado que no va a haber

en los partidos que restan para que finalice la temporada de liga y antes de ayer también con los mismos argumentos expresados por la ministra darias

de baloncesto se va a disputar en polonia a puerta cerrada los últimos días de mayo

de que comience la eurocopa de fútbol señor barrio no nos critique por haber sido coherentes y responsables gracias